bueno estamos hoy aquí planteando una proposición de ley debido al incumplimiento del gobierno vasco del mandato de esta cámara

a derogar el decreto nueve barra dos mil doce a levantar la suspensión del derecho de indemnización por jubilación anticipada de los profesores

y en caso de que no llegara a un acuerdo con ellos que nos remitiera un plan a este parlamento para estudiarlo y

no sé si es por la prepotencia del gobierno o cuáles son los motivos pero es evidente que cuando el gobierno incumple las propuestas

de ley que es simplemente de justicia hace ocho años el gobierno vasco decidió suspender determinados derechos

que tenían funcionarios unos en un sentido otros en otro debido a la crisis económica

no los que el partido popular que nunca ha estado en el gobierno vasco acordó con los sindicatos ahora todos entendimos que en aquellos momentos

evidentemente todo el mundo tenía que hacer ciertos sacrificios incluso se rebajaron sueldos de funcionario se congelaron subidas de sueldos hubo muchas más medidas bien algunas de esas medidas se han ido corrigiendo pero otras no se han ido corrigiendo

y hay que recordar que esa indemnización acordada no era un trato que el gobierno vasco

si lo daba o no lo daba porque le pareciera bien o mal era un acuerdo que tenía con los profesores no solo de la pública que es de los que estamos hablando ahora

que por cierto sí han seguido cobrando esa indemnización del gobierno vasco y sin embargo los profesores de la pública han tenido ese derecho

vía leyes de presupuestos bien el parlamento como digo hace ya bastante tiempo instó a varios gobiernos a derogar esta situación a arreglarla a no ir acumulando la deuda que se estaba creando con esos funcionarios

a día de hoy para que la bola no se hiciera mayor incluso nosotros se lo planteamos al gobierno vasco en las dos negociaciones de presupuestos que tuvimos

bien qué ha ocurrido en los dos últimos años en los dos últimos años en boca del propio gobierno del propio lehendakari del consejero de hacienda

más ingresos de los previstos y por lo tanto parece lógico que aquel personal que fue discriminado por este gobierno y por anteriores gobiernos recupere los derechos que tenía

lógica pero claro cuando el gobierno vasco se sigue negando y se sigue negando a cumplir su obligación

nos ha enviado del criterio con esta proposición de ley la verdad es que no tiene desperdicio porque párrafos

oponerse son muchos y variados pero solvente no es ninguno en el primer punto de la oposición del gobierno

pues no sé a quién creen que estamos engañando nosotros estamos diciendo que la suspensión de derechos acordada hace más de siete años se levante creo que es muy claro

en un reducido número de sentencias no nos apoyamos en ninguna sentencia ni a favor ni en contra ni de ningún tipo este parlamento en sucesivas leyes de presupuestos ha acordado mantener la suspensión de unos derechos

perdón lo pensábamos antes pero lo curioso es que el partido nacionalista vasco lo pensaba mucho antes porque el partido nacionalista vasco estaba a favor de este hace siete años y voto a favor de esto

ahora bien estaba en la oposición y a lo mejor eso hace variar algunas posturas nos dice

que claro que esta proposición de ley marca tercer argumento del gobierno de cara al acceso a la jubilación marcan los criterios de la negociación colectiva del personal no no

décimos que se cumplan los acuerdos de la negociación colectiva aprobada hace ocho años que los cumplan no décimos por dónde tienen que ir ustedes en su negociación colectiva décimos que lo que

que es muy simple luego nos dicen que claro que no han conseguido negociar que los sindicatos que representan al personal funcionario tal claro es que estas personas afectadas por cierto quiero saludarles desde aquí

claro ya no son personal funcionario ya no son personal funcionario y como no son personal funcionario pues los sindicatos en fin defienden los intereses de los que sí son personal funcionario y me voy a referir a ello ahora

curiosa que nos dicen que es que se incumple la regla de gasto y aquí señor lehendakari tengo que decirle en fin que teniendo un consejero de hacienda que ha reconocido públicamente en este parlamento que la regla de gasta la han incumplido cuando era necesario

en fin tiene su cosa pero es que encima no la incumplimos oiga

doscientos cincuenta millónes de euros doscientos cincuenta millónes de euros que van a tener que pagar a los empleados de osakidetza esto supone mucho menos

de euros ha dejado de ejecutar este gobierno en los dos últimos años

de euros señor lehendakari cuando encima nosotros lo que estamos planteando en esta proposición de ley es que se cumpla el acuerdo que aprobó este parlamento hace un año porque ni siquiera le estamos planteando

el año que viene todo el dinero que se les debe estamos planteando que se pague en tres años en tres años señor erkoreka no en uno no en uno que podarían hacerlo en uno con los datos

y por último nos dicen que claro que es que la iniciativa del grupo proponente es demagógica

que están haciendo ustedes del personal y expersonal del gobierno vasco

planteamiento demagógico del partido popular este dinero que ustedes reconocían hace siete años que se debía a los profesores

qué hacían y nos dice que hay que acordar con la representación del personal empleado oiga acuerden ustedes

esto puede suponer y encima ya es echar a los funcionarios en contra de los exfuncionarios tiene su gracia si no fuera triste que nos digan

para subir el sueldo de los funcionarios para ampliar las aportaciones a las epsv no hay que pagar las indemnizaciones que se deben a los profesores este es el planteamiento de su de la oposición de este gobierno a esta proposición de ley

este es un tema curioso señor lehendakari porque el pnv votó a favor de esto hace siete años

todos los grupos estamos de acuerdo con esto y sin embargo el gobierno va a votar en contra no solo va a votar en contra el gobierno lleva un año incumpliendo un acuerdo de este parlamento en esta materia

que recapaciten que cumplan sus obligaciones con el personal del gobierno vasco y si no les gustan las obligaciones que tienen

que se enteren los funcionarios que se les quitan por ley no que se suspenden indefinidamente eskerrik asko damborenea jauna

denoi desde elkarrekin podemos hemos decidido no solo

de voto a favor de esta proposición de ley que se plantea sino también salir brevemente a defenderla

consideramos que esta proposición de ley es una proposición de ley no solo de un grupo parlamentario de esta cámara sino sobre todo es una proposición de ley de las trabajadoras y los trabajadores afectados y de la asociación

presentes aquí a los que aprovecho para saludar que

muy insistentes en la defensa de sus derechos y que son los que han posibilitado en última instancia

en este caso defendiendo que salga adelante la tramitación de esta ley para que puedan recuperar sus derechos que yo voy a volver a describir como de

en otra ocasión ojalá no estuviéramos aquí ojalá no hubiéramos llegado a este punto el gobierno vasco hubiera decidido ser valiente afrontar esta situación y sentarse en serio a negociar con las trabajadoras y trabajadores

han mostrado su disponibilidad a negociar esta cuestión pero lo cierto es que y ya se ha dicho por parte del señor damborenea un año después también de aquella pnl que trajo si no recuerdo mal la señora

el parlamento vasco por mayoría el gobierno no ha afrontado esta cuestión y es una cuestión pendiente se dijo en aquel anterior debate que los derechos de estos trabajadores y trabajadoras no habían sido recortados

y no se recupera y no se sabe cuándo se va a recuperar y se nos dice que hay problemas presupuestarios para aplicar

pues llámese como se quiera llamar pero lo que se está buscando es que esto efectivamente sea un recorte y que muchas y muchos de estos trabajadores jamás recuperen esos derechos

de la crisis a nosotros nos parece que el gobierno no lo ha afrontado y que el parlamento finalmente va a aprobar hoy que se

que tal vez pueda permitir que se recuperen esos derechos más allá de todo esto nos parece a nuestro grupo parlamentario extremadamente grave que con la escusa de la crisis con la

de los problemas económicos que efectivamente podía haber en aquellos años dos mil once y dos mil doce los gobiernos y de manera especial en aquel caso un gobierno socialista un gobierno que se dice

utilicen políticas anti obreras políticas de recortes a derechos de los trabajadores para afrontar esos problemas económicos en nuestra opinión este tipo de políticas serían las últimas que debería afrontar un gobierno

para poder dar la vuelta a situaciones económicas complicadas porque hay políticas alternativas porque si se tiene que recortar

porque si hay que apretar el cinturón como se suele decir nosotros somos partidarios de que los recortes a los trabajadores sean la última opción y no fue el caso pero es que además estamos en otra coyuntura económica y política diferente estamos

bastante más favorable que la de aquellos años y estamos viendo cómo

esa suspensión de derechos y cómo más allá de esto vemos que no hay una voluntad cierta más allá de que luego cuando oímos a los portavoces de los grupos

la voluntad sí que parece ser que es de solidaridad con los trabajadores pero lo cierto es que están en el gobierno y no se afronta esta situación y sigue este recorte

en cuanto a sus reivindicaciones por lo tanto nosotros vamos a votar a favor defendemos sin ningún tipo de ambage la proposición de ley

que se presenta hoy y esperamos que los trámites sean lo más acelerados posibles porque creemos que es posible hacerlo y nos daría miedo

no posibilitase que estas trabajadoras y trabajadores viesen

aplicando en sus derechos además pensamos que este recorte de derechos es un incumplimiento por parte del gobierno vasco

de unos acuerdos que firmó un anterior gobierno pero que pensamos

haberse mantenido en vigor porque parte de estos derechos procedían como saben todas ustedes de un acuerdo con los sindicatos y nosotros pensamos que los acuerdos están para cumplirse y por lo tanto apelo de manera especial al partido socialista que hoy es miembro del gobierno pero que entonces quien gobernaba y que firmó aquellos acuerdos con los sindicatos y que luego fue también quien suspendió esa parte de aquellos acuerdos con los sindicatos

se trata de que los gobiernos progresistas o los gobiernos de izquierdas no solo lo sean en el papel

políticas progresistas y políticas de izquierdas y por lo tanto si a nosotros nos parece que en un momento de crisis económica aplicar este tipo de recortes contra trabajadoras y trabajadores no es la opción por la que debe optar un gobierno progresista en un momento

al menos en los grandes números está superada nos parece que no es

que un gobierno en el que participa el partido socialista siga manteniendo aquellos recortes por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de esta

y aprovechamos para hacer ese llamamiento los gobiernos no son de izquierdas o de derechas porque los partidos que estén en ellos digan que son de izquierdas o de derechas incluido mi propia coalición o mi propio partido lo son por las políticas

este recorte es un recorte de derechas es un recorte anti obrero contra los trabajadores

llámese socialista llámese liberal llámese comunista y por lo tanto nosotros pensamos que se tiene que poner fin a esta situación y votaremos a favor

gracias presidenta bienvenidos a los representantes de

que viene ya de largo desde hace más de siete años como se recordaba

en contra de esta propuesta pero entendemos la situación que afectaba a estos trabajadores y pensamos que probablemente cuando hace ya un año se aprobó en este parlamento una proposición que instaba a abrir una mesa de negociación

porque tarde o temprano había que darle solución puesto que el derecho no se había suprimido no se había abolido estaba

suspendido probablemente hubiéramos ganado un año no ha sido posible y hoy con la aprobación de esta proposición de ley se abre este periodo en el que

ese acuerdo básico que dé satisfacción a todos acuerdo que insisto podía haberse intentado hace ya un año porque había disposición nos consta a todos

que por una razón y otra no fueron aceptadas en su momento y

presupuestario puede plantear problemas de equilibrio pero es cierto también que cuanto más

el problema económico se alarga y se acentúa en el tiempo por lo tanto puesto que se ha aprobado esta proposición de ley lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es empezar cuanto antes las negociaciones con los representantes de los afectados

cumplida cuenta y aplicación de dicha proposición de ley muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak larrauri andrea zurea da hitza

eusko jaurlaritzaren iritziaren zentzu berean en concreto mañana hará un año que debatimos una proposición no de ley con el mismo objeto

de tres de mayo de dos mil dieciocho y al criterio emitido desfavorable por el gobierno vasco

en cualquier caso al igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores queremos expresar todo nuestro reconocimiento todo nuestro respeto y reconocimiento social

entendemos que al igual que todo el personal del sector público vasco que ha tenido o tuvo acceso a jubilarse anticipadamente desde el año dos mil doce no solo

en la proposición de ley aunque este sea el colectivo mayoritario que se hayan podido sentir perjudicados por esta medida una de las medidas contenidas en el decreto nueve barra dos mil doce del treinta y uno de enero medida reiterada sucesivamente o sea en las

leyes presupuestarias apoyadas por el grupo hoy proponente recordar que nuestro grupo parlamentario se opuso en su momento a esta medida porque

su recuperación con carácter retroactivo como pretende como plantea la proposición de ley supone un impacto económico multimillónario inasumible en este momento para las arcas públicas

a toda la plantilla de este sector publico que además supondría el incumplimiento de la regla de gasto y la imposibilidad de continuar con mejoras ya comprometidas para todo el personal público como puede ser

permisos de paternidad maternidad políticas de igualdad en definitiva lastraría la gestión de las políticas personal de este gobierno y este gobierno

de la función pública vasca es cierto que la mejora de la situación económica y de la recaudación ha permitido en los últimos ejercicios mejoras en las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas del sector público de la comunidad autónoma de euskadi como

incrementos salariales retomar aportaciones a itzarri pago del cien por ciento de las retribuciones en las it retomar el contrato relevo muchas mejoras

públicas pero no es cierto que esta mejora en la situación económica y en la recaudación permita la recuperación con carácter retroactivo de todas estas medidas

ello supondría un coste económico para las arcas públicas en ninguna además puntualizar que en ninguna de las leyes presupuestarias que han prohibido estos pagos se reconocía

a diferencia de lo que sí se preveía para la paga extra de dos mil doce

ha reconocido de momento el derecho al cobro con carácter retroactivo

por otro lado supondría esta proposición de ley plantea un doble agravio comparativo por un lado respecto a las otras medidas que se ha dicho

y dentro del propio personal efectivamente es un agravio comparativo cuando personal que ha tenido acceso que ha tenido derecho a acceder a jubilarse anticipadamente no lo ha hecho y

conociendo la normativa que ya estaba en vigor además efectivamente también interfiere en la negociación colectiva

y desconoce los acuerdos alcanzados desde el dos mil doce con la representación sindical como el contrato relevo

esta propuesta de haberse planteada debería haberse planteado de forma conjunta en la tramitación de las leyes presupuestarias pero en esas ocasiones o no se ha pedido

y en esas leyes presupuestaria sí que se han dado mejoras de las condiciones laborales para la función pública vasca es curioso el consenso alcanzado entre grupos tan distintos entre grupos tan antagónicos

la responsable y equilibrada política de personal y presupuestaria de este gobierno
y si se quiere materializar esto habrá que decidir de dónde se quita para poder pagar esto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

maría postgraduada investigadora contra el cáncer de la universidad del país vasco cuatro años trabajando quince horas al día y en junio se queda en paro pero para julio ya ha conseguido un empleo porque al ser de iparralde no tiene familia en bizkaia y no puede sobrevivir sin un salario sea indigno se va a dedicar a servir copas lógicamente dejará su carrera como investigadora de lado y esto según la señora artolazabal el pasado viernes

portero de una discoteca por diez euros la noche como no podía ser de otra manera para la señora artolazabal

y en todas las ciudades de nuestra comunidad autónoma y aunque a veces cueste mirarla a los ojo

mirar a otro lado por parte de las instituciones es esta la realidad y esto es lo que pasa en las vidas de miles de personas jóvenes preparadísimas que tenemos en euskadi lo decía en la intervención del último pleno de control en el que interpele a la señora artolazabal que ser joven en euskadi significa incertidumbre

la incertidumbre de si nos echarán a la calle porque alguien con los bolsillos llenos diga que salimos caros la incertidumbre de si podremos emanciparnos o la de si podremos formar

y decíamos en ese sentido que la solución a la realidad actual no pasa por poner parches para curar heridas de un sistema que se desangra de arriba abajo para la juventud

porque las dificultades de la juventud para desarrollar un proyecto de vida no son coyunturales son sin duda estructurales la coyuntura económica y laboral de la actualidad afecta a nuestras condiciones de vida y afecta especialmente en la juventud

pero hay que mirar a la luna no hay que mirar al dedo y hasta ahora la única respuesta que ha habido por parte de las distintas instituciones en su mayoría por parte del gobierno vasco

poner tiritas que traten de revertir y de paliar cierta cronificación de la precariedad en la juventud pero esto lamentablemente y a tenor de los datos no ha funcionado

sin embargo ha sido fiel reflejo de cómo este gobierno ha entendido o entiende

aislado del resto de la sociedad un colectivo que ni existe para el noventa y cinco por ciento de las políticas públicas de este gobierno y es una pena pero esta es la realidad

se les trata de dar respuesta a través de planes de juventud que no funcionan a pesar de los kilos de maquillaje con los que este gobierno los viste y por eso pedimos desde elkarrekin podemos un cambio de enfoque y revisar el impacto de las políticas en general en la juventud y esto hasta el momento al menos al gobierno le ha dado absolutamente igual y no se ha hecho nada de esto

porque no lo ha entendido o porque no ha querido entenderlo porque mientras el gobierno vasco privatiza la educación la juventud tiene que dejar sus estudios para poder pagarse un alquiler abusivo porque mientras este gobierno

hasta los treinta o treinta y cinco años en casa de los aitas o porque mientras este gobierno presenta con grandísimos titulares programas de retorno de talento que consiguen traer a euskadi la friolera de nueve personas en cuatro años nueve personas en cuatro años diez mil jóvenes tienen que marcharse obligados al exilio

la vida y en elkarrekin podemos cuando hablamos de juventud queremos hablar también de nuestro modelo productivo porque mientras el gobierno vasco

las personas jóvenes tienen que trabajar en el turismo o en la hostelería sectores precarizados que no permiten un proyecto de vida a nuestra juventud porque es la ineficaz política del gobierno vasco la que hace que los jóvenes estemos inmersos en incertidumbre

vasco y por eso lo que pedimos en esta moción parece tan sencillo como revolucionario por qué pues porque las decisiones políticas y económicas

porque se ha renunciado a legislar para el hoy poniendo las bases del mañana y en este sentido creemos muy importante

hemos llegado a una enmienda transaccional en primer lugar es necesaria una definición una definición de lo que son las personas jóvenes de euskadi no puede ser que a veces persona

con las asociaciones de personas jóvenes existentes en euskadi

vasca en segundo lugar evaluar el impacto de las políticas públicas en la juventud y esto es imprescindible porque si no sabemos

de nuestras instituciones en la juventud jamás lograremos como sociedad dar respuestas adecuadas a los problemas que tiene nuestra juventud qué sentido tiene por ejemplo

si a la vez la política industrial del gobierno vasco hace que nuestra industria

como el turismo y la hostelería como decía antes es decir mientras una política trata de poner parches a una situación la otra desangra aún más a la juventud y la envía directamente al rincón de la precariedad y esto no tiene sentido alguno

por eso hay que medir cuál es el impacto de todas las políticas en la juventud porque solo así tendremos el camino para entender cómo afectan y podremos dar soluciones que miren al futuro

públicas de la comunidad autónoma de euskadi de modo que se incluya la mirada sobre la juventud como un elemento transversal en euskadi algo trascendental si queremos que toda política pública afecte de manera positiva a la juventud y sobre todo

a la juventud y finalmente pedimos que se segmente por edades todos y absolutamente todos

simplemente porque esta es la única manera que nos permitirá conocer los resultados específicos de la categoría de edad correspondiente a las personas jóvenes como entenderán

si queremos poner a la juventud en el centro de toda política pública y como decía antes hemos llegado a una transacción con los dos partidos que han enmendado la moción y la verdad aunque en todo acuerdo hay que ceder

con el paso que damos aunque creemos que llegamos tarde pero bueno esta vez por lo menos

que vayan a llevarse a cabo y que se hayan llevado a cabo y acabo con algo que ya he dicho pero que no puedo dejar de decirlo una y otra vez ya que

de esta iniciativa y lo que tantas y tantas jóvenes están pidiendo

de las instituciones tiene un impacto real en la vida de las personas jóvenes y es obligación de las instituciones públicas en este caso del gobierno vasco

en consecuencia porque es necesario un cambio de enfoque que permita analizar la situación actual mejorarla para así dar soluciones integrales a la juventud eskerrik asko

señorías buenos días a todos y a todas ya se ha contextualizado un poco en la intervención del proponente cuál era la causa de la que trae esta moción que es aquella interpelación en la que hizo una descripción el señor bollain de

de la juventud vasca y también su opinión sobre las políticas que lleva a cabo la administración vasca la propuesta que nos presentó en forma

que usted establecía se referían

de personas jóvenes se refería a la mirada de la juventud en las políticas públicas que deriven o que salgan del gobierno vasco y a que

por segmentos de edad yo entiendo y discúlpeme que esta cuestión sí estas iniciativas eran propuestas que se realizaban

hay unas políticas integrales de juventud que se incluyen en los planes de juventud desde el año dos mil doce y hay una evaluación de esas políticas de juventud cuestión distinta es la opinión

dichas políticas pero a lo mejor me sorprendía un poco las propuestas para la interpelación que se produjo

entre usted y la señora consejera pero bueno en todo caso sobre las propuestas que usted entendía que podían mejorarse yo creo que hemos llegado a un acuerdo y es lo que en este momento

de esas políticas públicas establecidas en el instrumento para

que no se haya hecho nada más justo hace un año

sobre empleo juvenil y sobre unas medidas relativas al empleo juvenil que fueron transaccionadas y se están intentando implementar por el gobierno vasco que

la empleabilidad y los planes de empleo para los y las jóvenes vascas y a mí me pareció también formó su grupo parte de dicho acuerdo

manteniendo porque sí es cierto que lo que voy a compartir con ustedes lo que decía en la interpelación y lo que ha manifestado yo creo que la juventud

a la de fuera de euskadi y que tenemos un diagnostico compartido

a la misma y que son causas estructurales y no solo coyunturales las que las definen

hay que hacer políticas activas de todas las administraciones públicas que incidan en este sector

lo que si me apura en los últimos meses incluso ustedes y nosotros también no solo aquí sino en el gobierno de españa hemos tenido oportunidad

sentido en el de favorecer la situación de la juventud vasca por tanto

en el que los y las jóvenes vascas destaquen por una situación

a las demás la maldición de los y las jóvenes sigue siendo la misma o paro o precariedad y es cierto que baja la tasa de paro

de precariedad absoluta en los empleos de los y las jóvenes y que eso es una cuestión que no puede discutirse

vascas a la hora de afrontar esas soluciones estructurales que pasan por acuerdos también interinstitucionales porque no solo depende de las competencias que tenemos en el país vasco el poder

a las mismas además le decía la consejera yo estoy de acuerdo en las dificultades para la emancipación el principal problema de los y las jóvenes vascas la emancipación y la vida independiente decía la consejera que la carestía de la vivienda

más fuerte debido a que se gastaba la mitad del sueldo para la compra y más de la mitad para el alquiler pero claro es que no es que la carestía de la vivienda es que estamos hablando de un sueldo de mil euros

un sueldo bastante precario que es una de las fundamentales brechas que euskadi con otros países

lugares de la unión europea mantienen con los países más punteros de europa es cierto que no puede haber acceso a una vida independiente no solo porque este cara la vivienda sino porque hay un mantenimiento

que además se realizan en condiciones de precariedad sin embargo yo creo que la inestabilidad

por las jóvenes en este caso aquí fuera de aquí no siempre es el signo principal de los partidos políticos hablaba de que son los grandes olvidados acabamos de tener una campaña electoral tendremos otra dentro de quince días

y mucho de los más mayores y precisamente eso también en la calle nos lo dicen a todos los responsables políticos porque la situación

a los y las jóvenes que están en esa situación y es el que está creando la desafección política y también

la no confianza en las instituciones pero no solo usted dice en la interpelación en las instituciones yo creo que la desafección política ya afecta a todas las fuerzas políticas de esta cámara ya no quedamos

se mantiene insisto en que las medidas

los mecanismos para incluir esa mirada de la juventud en todas las políticas públicas por supuesto que nos parece aceptado y así se lo hemos hecho costar

para la revisión de la próxima ley de juventud y también que se mantenga esa evaluación y con mejoras de las políticas integrales que se apliquen desde el dos mil doce por parte del gobierno vasco para la población joven pero usted sabe y yo conozco que con independencia de que sí entiendo

en el mismo pleno sobre empleo juvenil sí es cierto que esos planes de juventud van destinados fundamentalmente

por el acceso al empleo y la dignificación en el empleo esos planes deben de ser compartido con consensos y acuerdos no hay soluciones mágicas

en materia laboral la educación es el arma fundamental para dignificar el empleo juvenil pero sobre todo también la regulación de las condiciones en las que esos jóvenes esas jóvenes hacen

resolver en fechas muy próximas gracias eskerrik asko romero

zenbat berrikuntza daude hacer una definición de las personas jóvenes de euskadi que incluya una delimitación por edad bueno puede ser interesante pero eso vendrá en la ley y tendremos tiempo a debatirlo a ver qué aportaciones hacen las diferentes asociaciones juveniles y la necesidad que tenga ese tema

e incorporar medidas específicas para que las personas jóvenes de euskadi puedan mejorar y que sea transversal y para eso tenemos el cuarto gazte plana nik uste dut laugarren

eskatzen duzu segmentar por edades los datos que se publiquen por las instituciones para ver los resultados específicos

sinestea eta voltaire esaten zuen que lo mejor es enemigo de lo bueno

gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías buenos días a todos

de empleo y políticas sociales sobre la situación que usted pintaba

de los jóvenes vascos de cara fundamentalmente a tres aspectos a la búsqueda de un primer empleo a que ese empleo de calidad y no un empleo precario y de cara a poder emanciparse e iniciar un proyecto de vida individualmente o en pareja

hasta ahora su proyecto personal el discurso que usted nos hizo efectivamente nos colocaba en una situación que todos conocemos que es de unas tasas de paro muy elevadas

de las personas adultas de unas condiciones de trabajo francamente malas y de la imposibilidad prácticamente para todos los jóvenes de salir de casa abandonar el hogar

la consejera en un discurso que a mí no me pareció especialmente convincente con muchísimos datos encima de la mesa obviamente los que avalan la gestión

nos dijo que las cosas podían mejorar pero que estaban bastante bien insisto a mí no me convenció pero parece ser que a usted sí le debió convencer porque la iniciativa que nos ha presentado después de aquella interpelación

es que se nos faciliten todos los datos segmentados por edad aquellos datos que facilite el gobierno del general de sus políticas le insiste también al gobierno en que haga una valoración de todas sus políticas públicas sobre los jóvenes es decir estamos contentos

sobre ese segmento de la población y finalmente o en primer lugar aunque yo lo trate en el último

le pedía al gobierno que hiciera el trabajo que tienen que hacer los grupos parlamentarios a la hora de elaborar o de tramitar el proyecto de ley de juventud que llegará a la cámara que sustituyendo a los grupos parlamentarios que fuera el gobierno quien nos definiera qué es la juventud

la juventud a mi francamente la iniciativa me pareció vamos a dejarlo en poco ambiciosa

yo no lo soy pero me preocupa tanto o más que a usted la situación porque sí tengo dos hijos que son jóvenes y que se enfrentan a un futuro laboral complicado difícil incierto que parten de una base de un sistema educativo que ya no es el trampolín que era antes que ya no tiene una excelencia en la calidad que les permita

y que efectivamente van a tener problemas para conseguir emanciparse por eso a mí este tipo de políticas me preocupan y creo que las políticas del gobierno

a esos índices de paro que superan en el doble

de las personas adultas especialmente en el desempleo entre las mujeres por eso no enmendamos su iniciativa señor bollain porque nos parecía que

nos facilite más datos ni que nos cuente cómo afectan sus políticas en general a lo que denominamos la juventud vasca pero

perdón no creo que esa sea la solución a los problemas que tienen los jóvenes vascos por eso nos quedamos ahí y hoy cuando veo además que ha llegado a un acuerdo con el gobierno para que efectivamente y simplemente hagan eso y usted apoya que se

haciendo las políticas sobre los jóvenes o que afecten a los jóvenes en la misma línea que se vienen haciendo en toda la legislatura pues entonces creemos que todavía la ambición de su iniciativa es mucho más pobre de la que nos temíamos cuando la leímos publicada en el boletín por ese motivo señor bollain nosotros simplemente

y buscaremos iniciativas de todos los grupos de la cámara que sean efectivamente la solución a los problemas de los jóvenes vascos gracias eskerrik asko

erakusten duten bezala no llega al trece por ciento el porcentaje de esta parte del país de jóvenes que consideran que van a ser más felices que sus progenitores que sus padres y madres y en cierta medida es una condena a toda una generación y la señora gurrutxaga ha citado antes a voltaire y yo voy a traer a colación a einstein porque no podemos

poniendo en marcha los mismos planes ya que así y si es así y de ese modo

resultados y a la vista está que están muy lejos de ser eficaces desde euskal herria bildu lo venimos repitiendo por activa y por pasiva es el momento de dar un salto cualitativo a través de políticas significativas de políticas

efectivas sin escatimar en esfuerzos ni en recursos quizás haya que retrasar otro tipo de inversiones ya que es hora de invertir en nuestros y nuestras jóvenes de lo contrario estamos

tal y como lo dictaminaba ese estudio que realizó lanbide que publicó lanbide y que enseguida retiró lanbide puesto que suponía un suspenso en negritas y en mayúsculas de las políticas de juventud llevadas a cabo por el gabinete

gehiengo batez voluntad de amplios acuerdos en materias de juventud es lo que necesitamos ya que la situación lo requiere pero no acuerdos como el de hoy que sirvan

una postura un tanto autocomplaciente y ya que está a la vista de los resultados que están siendo completamente insuficientes dichas políticas de juventud acuerdos amplios es lo que debemos buscar que suponga moverse

acuerdos que supongan mojarse a este gobierno y acuerdos que atendiendo a la realidad

nuevas iniciativas y en ese sentido hemos abordado hoy la iniciativa que elkarrekin podemos ha traído a debate

una iniciativa que está muy lejos de plantear soluciones a la juventud

aquí por boca de otros portavoces y que a nuestro entender nos lleva a escenarios previos consensuados a los que habíamos llegado en esta cámara en cuestiones

es en el diagnóstico la precariedad y las dificultades de las personas jóvenes en el acceso al mercado laboral a una vivienda digna etcétera precariedad absoluta decía la señora romero

por las que pasa la juventud decía la señora gurrutxaga también el señor arbulo y usted mismo señor bollain usted planteaba hoy aquí un discurso que nada tenía que ver luego con el planteamiento y la

pero muchas veces en política no es tan importante el contenido sino la disposición y nosotros y nosotras aun sin ser decisivos vamos a votar favorablemente a uno de los puntos aunque como digo poco aporta solucionar los problemas de la juventud porque

el de definir qué son personas jóvenes y qué no acaso sería un debate la mayoría de edad o no y ustedes sin embargo lo que hacen es plantear y además el gobierno se la ha metido torcida con

poniendo una cuestión de límites de edad para poder obtener derechos como juventud con el segundo de los puntos bigarren puntuari dagokionez

uste delako horrela egitea eta zentzu horretan lo dicho vamos a pedir la votación por puntos

medidas específicas sobre juventud como elemento transversal hay camino que recorrer

que es lo que necesitamos dejando de lado luchas partidistas posicionamientos electorales ya que la situación lo requiere se agota el tiempo como decíamos ha llegado la hora es el momento de dar un salto cualitativo a través de las políticas significativas efectivas y determinantes que necesitamos para dar respuesta
a los problemas que la juventud tiene en este país eskerrik asko

eskerrik asko berriz ere presidente andrea bueno señor estarrona lehenik eta behin hasteko el gobierno vasco no sé cómo has dicho no nos la metido

porque torcida pues torcida el primer punto de la moción es realizar una definición de las personas jóvenes de euskadi que incluya una delimitación por edad

que ya lo estábamos pidiendo nosotras es verdad hemos decidido dar un paso hemos decidido dar un paso en una dirección

no es la solución pero creo que es un paso y que realmente es un paso ambicioso

datuak ez ditut erabili y el problema está ahí que yo no hablo de datos el problema no son los datos no es la situación que sea el cincuenta por ciento que sea el cuarenta y cinco por ciento que sea cincuenta y cinco el problema es

no se tiene en cuenta a la juventud y yo cuando hablo de juventud no hablo

o cuando hablo de datos desagregados por edades no hablo de los datos

yo hablo de todo y lo dejo

no hay novedades desde el dos mil doce ya se evalúa el impacto de las políticas públicas en los gazte planas pero yo

la señora artolazabal no lo entendió el viernes pasado no sé si ustedes han llegado a entenderlo yo hablo y en la transacción queda claro evaluar el impacto las políticas públicas realizadas por las instituciones de euskadi en las personas jóvenes no de todas las políticas de juventud de todas las políticas públicas es decir y se lo preguntaba a la señora artolazabal la vez anterior alguien del gobierno le decía

si alguien se había preguntado cómo nos afectaba a la juventud

por parte de este gobierno o cuando le preguntaba a la señora artolazabal si tenía este gobierno datos

a pesar de tener la formación necesaria tendrán que trabajar en el turismo y la hostelería porque la política

sigue destruyendo datos estos son todas las políticas

los planes de juventud otro ejemplo el departamento por ejemplo de la señora tapia ha evaluado el impacto que por ejemplo tiene el cierre de la naval sobre la juventud eso es evaluar todos los impactos

sectores que dentro de veinte años no existirán o en el mejor de los casos estarán en declive y una y otra vez pospone y ralentiza por ejemplo

a los retos climáticos tecnológicos sociales y distributivos del siglo veintiuno lo que está haciendo

entera porque llegaremos tarde llegaremos corriendo y deprisa y llegaremos sin planificar a una transición que es inevitable y que va a penalizar a los países que se queden rezagados y va a penalizar a los jóvenes y a las jóvenes que serán las personas que en ese futuro tendrán bueno pues tendrán que

a esos retos no esto es poco ambicioso que todas las políticas públicas de este gobierno

yo creo que no y de hecho es lo que más de un millón y medio de jóvenes estuvieron pidiendo y siguen pidiendo alrededor de todo el mundo

no es poco ambicioso esto es muy ambicioso lo que no sé es si ustedes lo han entendido y si están dispuestos a hacerlo

que lo mejor es enemigo de lo bueno sabes qué le digo yo sabe qué le digo yo señora gurrutxaga que la autocomplacencia es enemigo de la mejora eskerrik asko

brevemente yo creo que finalmente sí se ha centrado el debate y compartimos

que venga o sobre pero es cierto que no espera

creo un acuerdo político en el que dejáramos al margen los intereses electoralistas y los partidistas y que centraba sobre todo en los grandes problemas de la juventud que están evaluados y diagnosticados y que se circunscriben

fundamentalmente porque lo hemos dicho todos y todas en las dificultades que por salario tienen para acceder a la vivienda y

autónoma hay una juventud hay un sector de la población de la que nadie habla digo porque

nadie ha hablado de nosotros porque no hablan tanto el paro juvenil porque solo hablan los y las políticas de pensiones y por eso

de la crisis económica ha montado sobre ellos muchas de esas responsabilidades de las instituciones públicas yo creo que es una llamada de atención que debemos de tener en cuenta todas las fuerzas yo creo que todas tenemos que estar en esa disposición efectivamente como decía el señor estarrona de también mostrar la disposición para el acuerdo

de medidas que puedan incidir en esta o en cualquier otra cámara sobre esos esas razones fundamentales o estructurales de la precarización

estandartes o razones en la precariedad laboral

para adoptar y trabajar esas medidas insisto

el objetivo acabar con la precarización laboral en todo el mercado laboral y especialmente

y los jóvenes muchas gracias eskerrik asko romero

la presentación de su iniciativa hoy poniéndonos cuatro o cinco casos de personas con nombres y apellidos con un currículum con un trabajo una ausencia de trabajo

debido a la falta de las políticas que pone en marcha el gobierno vasco yo no sé

o si es un genérico en el que todos hemos puesto cara y apellidos nombres y apellidos a esas personas porque es la realidad de la situación de la juventud vasca yo no sé si

le supone algo a esas personas si les va a ayudar en algo yo creo sinceramente que no yo le voy a poner otro ejemplo este no tiene caras este no tiene nombres y apellidos porque ninguna persona se va a encontrar en esa situación mire yo le voy a hablar del plan que hay una empresa vitoriana piense que yo soy alavés y a mí mi tierra me tira mucho y siempre tiendo a hablar de mi tierra porque

un proyecto muy interesante muy bonito sin ningún tipo de ayuda pública que yo sepa

cuatrocientos jóvenes que normalmente la gran mayoría de ellos están

y que tienen la oportunidad de pasar unos meses del verano trabajando en esa empresa

que van a percibir el salario del convenio uno de los convenios más altos que tenemos en euskadi

ese mundo y que ellos durante esas prácticas trabajo que realizan conocen la empresa y la empresa les conoce a ellos y eso abre muchas puertas a futuro

dentro de algunos dirigentes políticos ha hecho que por comentarios sin ningún tipo de fundamento técnico sin ningún tipo de responsabilidad a futuro

echando marcha atrás y empezando a poner ya no a levantar el pie del acelerador sino a colocarlo sobre el pedal de freno y esas prácticas de este verano

no van a tener la oportunidad de conocer esa empresa y ojo mucho más importante

porque esos currículums se quedaban ahí y en el momento en que se generaban puestos nuevos de trabajo se llamaba a esas personas para incorporarse ni una sola

soportan sustentan al gobierno sirve de nada para ellos y le digo por qué porque ninguna de las políticas que

porque cuando nos den los datos de la situación de esos jóvenes segmentados por edades ellos no aparecen en ningún sitio porque ni siquiera son desempleados

de verano trabajan y en ese momento se dan de alta en los datos no son desempleados señor bollain esta iniciativa sinceramente creo que para ellos

absolutamente de nada como muchas políticas públicas que se hacen desde este gobierno

para los jóvenes que aspiran a un empleo en el sector

no sirven gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

he de reconocerle señor bollain que usted hoy me ha hecho experimentar una especie de síndrome de gobierno porque me siento defendiendo un poco a este gobierno cosa que hasta generalmente no había ocurrido y

en muchas otras cuestiones en las que consideramos que debe revertir las políticas públicas que está llevando a cabo porque tal y como se comentaba

usted aquí habrá podido consultar que se habla del contexto demográfico se habla de educación se habla de empleo se habla de emancipación y vivienda se habla de

y en todos estos apartados se hace una segregación por edades

de la que se hace el análisis de la juventud de este país pero es que dentro de esos quince veintinueve como he dicho antes se hace una segregación

dice usted que hoy han traído aquí una iniciativa con mucha ambición y si tener ambición para ustedes es aprobar hoy aquí una iniciativa para la cual los grupos que sustentan al gobierno no han tenido casi ni que cambiar un punto y una coma si eso es tener ambición para ustedes creo que la juventud de este país no va a querer su dos iniciativas han traído ustedes esta legislatura relacionadas directamente con la juventud la primera lo único que ha quedado de aquella iniciativa

obligar al gobierno que no tenía recogido en las previsiones de su calendario legislativo traer la política de juventud y fue

presentó euskal herria bildu que presento la señora y compañera oihana etxebarrieta si esto es ambición la suya

pues bueno sin más hágaselo mirar porque tanto el gobierno como el partido popular

remata el peor año de su historia con el cierre de trescientos negocios

alguno de los considerados como peores años de la crisis económica sin embargo y desgraciadamente este titular en el que se califica

es de este año es de enero de dos mil diecinueve y hace referencia al último ejercicio vigente

dos mil dieciocho en opinión de una asociación de comerciantes fue el peor año

txikien kontura y también hay que mencionar el desmadre que ha existido en el departamento

ha advertido que se incorporaría con retraso por un acto que tenía pero el departamento ha sido

en los últimos tiempos es un departamento en que no solo ha habido un relevo en su cabeza

consejero que puede entrar dentro de lo normal pero es que un departamento en el que han cambiado los jefes de gabinete han cambiado los jefes de servicio ha habido salidas con portazos tenemos una viceconsejera que ha pasado desaparecida la mayoría del tiempo ni siquiera tenemos

la máxima autoridad de este gobierno en el ámbito del comercio es candidato

calidad de director de comercio con sus labores de candidato y es que no es único que ha sido candidato también el consejero

vemos que ha habido un departamento que no ha estado en absoluto centrado y no ha estado en absoluto a la altura de las necesidades

porque hay como decíamos un análisis de una situación mala hay un análisis de unas causas y lógicamente lo que nos corresponde es rematar ese análisis con la proposición

venido hoy a hacer necesitamos un esfuerzo conjunto un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía las asociaciones del sector los partidos políticos y las instituciones para dar

que está en la situación de debilidad que acabamos de mencionar no olvidemos que en cuanto a su dimensión económica el sector del comercio representa prácticamente el once por ciento del producto interior bruto y genera tanto mediante autónomos como empleados de empresas mayores

especialmente significativo dentro del conjunto de la economía pero es que además de su peso económico además de su dimensión cuantitativa

presenta y aporta una serie de valores añadidos una serie de intangibles que también son un valor a la sociedad más allá de la mera actividad mercantil los comercios

los comercios iluminan y dan seguridad a las ciudades los comercios permiten que en estos tiempos de virtualidad en las relaciones de redes sociales intangibles permiten crear redes sociales físicas de gente que anda por la calle que se cruza que se saluda que habla con su tendero que vive en contacto con los demás y eso sucede porque existe comercio y existen puntos de encuentro sociales vertebrados a través de ese comercio por su dimensión cuantitativa y por su carácter de aportación a la economía y también por este valor añadido por esta dimensión social del pequeño comercio

y con medidas decididas ya es conocido que nuestro grupo presentó la proposición para realizar un pleno monográfico sobre esta cuestión un pleno que se ha visto

retrasado por cuestiones de agenda y de calendario a una fecha posterior pero entendemos

una serie de medidas inmediatas que empiecen a aliviar la situación de un sector que de forma indisimulada y directa está pidiendo ayuda a las instituciones que está poniendo una y otra vez la situación delicada en la que se encuentra y está pidiendo políticas públicas decididas que le hagan frente a esta situación y por eso

proponemos la creación de un grupo de trabajo interinstitucional porque sabemos de la complejidad del sistema fiscal en esta comunidad entre todos los afectados para valorar la implantación

comerciales por su ocupación del espacio público y también por las externalidades de carácter medioambiental que generan y también proponemos que se estudie la forma de

que es un fenómeno que viene para quedarse que al igual que los centros comerciales también tiene su espacio en el sector del comercio y evidentemente tiene que tener un espacio

no se puede dar ventajas añadidas a este sector mediante una fiscalidad difusa

que abrasa de impuestos al pequeño comerciante y que prácticamente libera de ellos al que opera a través del comercio electrónico que además de no generar empleo los pocos impuestos que paga generalmente se pagan fuera es necesario estudiar esas medidas fiscales

y también en positivo sobre la posibilidad de mejorar la fiscalidad del pequeño comercio especialmente de aquellos establecimientos y comerciantes que se encuentren en situación de dificultad

es la protección del comercio tradicional del comercio que lleva más años funcionando porque tiene un plus como decíamos anteriormente de vertebración de la vida social incluso puede tener un propio valor cultural hay muchas tiendas que en sí mismas constituyen un patrimonio y esas tiendas tienen que tener algún tipo de promoción

algún tipo de reconocimiento y también en su caso de ventaja fiscal o económica que permita sobrellevar la situación de muchos de estos establecimientos que a veces y en la prensa periódicamente

se ven abocados al cierre por subidas bruscas de alquileres o porque no les llega por

que si hay tiendas tradicionales que llevan décadas establecidas y realizando su actividad y si encima además tienen algún tipo de patrimonio arquitectónico algún tipo de valor cultural

que el gobierno central deje de invadir las competencias de la comunidad autónoma vasca en materia de comercio pedimos también que se defienda el autogobierno y cuando décimos que el autogobierno no son solo cosas abstractas identitarias

tener la capacidad de regular aquí sobre aspectos que afectan a nuestra vida cotidiana

la competencia de comercio es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma vasca y sin embargo hemos visto

de gobiernos anteriores cómo se han tomado medidas invasivas en nombre de la libre competencia que han perjudicado al pequeño comercio que han apostado por la liberalización

de determinados ámbitos esas medidas se deben de poner en suspenso y se debe de pedir al gobierno

que deje de invadir o que no siga por la senda que han llevado gobiernos anteriores o de otro color en este caso

de invadir la competencia vasca del comercio pedimos y esto es un ejemplo de lo que acabamos de comentar pero por su importancia queríamos hacer un apartado específico al respecto que fijos en los periodos de rebajas fijos y limitados

y como corresponde al sentido que tenía el periodo de rebajas que no es estar todo el año de rebajas sino que las tiendas puedan tener

al final de esa temporada porque nos estamos acostumbrando a la cultura low cost y muchas de veces podemos decir que lo low cost nos gusta quién no cae en la tentación

lo que encontramos es el salario low cost los derechos low cost

cuando se está expulsando del ámbito del comercio al pequeño comerciante que busca generar unas condiciones laborales dignas y que busca hacer una oferta de calidad y se está promocionando

que precarizan el trabajo y que son las que efectivamente se puede permitir el lujo de estar siempre

y un último aspecto también importante y fundamental que para todo esto y para muchas cosas más que necesitamos implementar para muchas nuevas políticas que necesitamos desarrollar mediante una interlocución activa con el sector del comercio y por parte de las instituciones necesitamos recursos económicos necesitamos que exista una proporcionalidad

y los recursos que desde las administraciones públicas se dedica a promocionarlo y protegerlo en estos momentos lo que

está en condiciones de duplicar su presupuesto pero es que la sorpresa es que esta actividad económica del comercio

recibe por parte de las instituciones públicas la irrisoria cantidad de dieciséis millónes de euros al año para su promoción

se debe pasar y un plazo de cuatro años es un plazo prudencial para que se dé ese salto porque como decíamos es un sector económico y es un sector que presenta un valor añadido en otros

de la actividad total las instituciones dedican un porcentaje

el comercio quizás no dé titulares positivos quizás sea más agradecido dedicarse a promover otras áreas de la economía a salir en el teleberri inaugurando fábricas porque fabricas se van a estar inaugurando siempre lo haga bien

sea más interesante dentro del propio departamento de comercio y turismo sacar

aunque yo creo que también están perdiendo ya el control en el ámbito del turismo pero lo que es ingrato es salir a dar la cara cuando los resultados son los que son cuando los resultados son malos

que se sea consciente de que la gravedad de la cuestión es enorme y de que es imprescindible

vascos consideramos que el apoyo de las administraciones al comercio local debe reforzarse para intentar minimizar efectivamente la desventaja del comerciante local

lo hemos dicho incluso cuando se debatieron los presupuestos del departamento de turismo comercio y consumo pero le recuerdo que los presupuestos no se aprobaron cuando el sector estaba demás bastante satisfecho con la propuesta del gobierno vasco para el año dos mil diecinueve efectivamente el sector comercial supone el más del once por ciento del producto interior bruto vasco y tiene además una importante función de articulación social

el señor casanova y el departamento de turismo comercio y consumo ha ido incrementando los recursos presupuestarios

y ha planteado consensuadamente con el sector nuevos programas y líneas de ayuda en base a las necesidades planteadas por el propio sector y no podemos olvidar que además

de la regulación comercial y esa es una tarea que trasciende a la comunidad autónoma vasca trasciende al propio estado la normativa que viene de europa tiene un papel fundamental en la equiparación de las condiciones y de las reglas de juego para todo el sector del comercio porque si defendemos un empleo decente y sostenible en un sistema

de algunos porque todos todos deben de jugar con las mismas reglas de juego

algunos datos diferentes en el sentido de que adscriben a lo que comentaba antes el señor casanova por ejemplo en el primer trimestre de dos mil diecinueve la tasa de variación interanual del empleo en el comercio un cero coma dos por ciento y analizando los datos de forma segregada el comercio al por mayor mejoró un uno por ciento sin embargo el comercio al por menor descendió un cero coma seis por ciento en el sector de comercio en su totalidad aumentó el empleo en el grupo de asalariados

y sin embargo disminuyó en el grupo de autónomos un uno coma seis por ciento también en términos de consumo el proceso demográfico de envejecimiento

las necesidades y los hábitos de consumo varía en función de la edad

diferenciada de las nuevas tendencias tecnológicas en los distintos segmentos de edad abren a su vez juego complejo de necesidades y oportunidades de posicionamiento diferenciado para el comercio vasco por todo ello el comercio y sus diferentes manifestaciones se están enfrentando a cambios disruptivos que han llegado más de la mano de operadores globales que de otros agentes como puedan ser

y más concretamente respecto a la fiscalidad en el comercio los socialistas vascos hemos propuesto como lo hemos reiterado en varias ocasiones y debatiremos también esta circunstancia

analicen en el seno del órgano de coordinación tributaria la fiscalidad vinculada al comercio toda la fiscalidad vinculada al comercio

sí tiene un ámbito de establecimiento y aplicación autonómico pero no así el del comercio electrónico

el gran adversario del comercio tradicional está fuera de nuestras fronteras y por ello la gobernanza y la fiscalidad deben ser abordadas desde un enfoque

que son las que tienen en este sentido la capacidad de regulación y las posibilidades con las herramientas de la competencia y el freno a la elusión fiscal para conseguir que

requiere la superación de ámbitos autonómicos y nacionales para acordar y aplicar criterios fiscales a esos grandes operadores de la venta y la distribución comercial

tiene una firme apuesta por el pequeño comercio el comercio tradicional ese comercio que nos es próximo y prueba de ello son los programas de apoyo como hirigune destinados a incentivar estrategias zonales de cooperación de dinamización y de competitividad comercial o también el programa de nuevo cuño de emprendimiento comercial para personas autónomas como apuesta base de soporte para el rejuvenecimiento y el empleo de futuro en el comercio

que pretenden dar herramientas al comercio vasco para enfrentarse

a los operadores disruptivos impulsando la igualdad de oportunidades y el gobierno vasco en definitiva está haciendo un esfuerzo por la modernización y la innovación del sector

como de creación de una imagen y cultura empresarial coherente con las nuevas tendencias sociales un papel que refuerce su atractivo ante el consumidor

en tanto que actividad actual una actividad creativa y además independiente y se ha prestado una especial atención a la competitividad empresarial

también a las iniciativas y programas que impulsan la digitalización y la unicanalidad que el crecimiento del comercio online trae consigo y también

hay una gran implicación de los programas de comercio del gobierno vasco con la sostenibilidad de los entornos urbanos impulsando la colaboración del comercio con el resto de actividades terciarias

optimizándose también las nuevas oportunidades que surgen por ejemplo

emergente y se fomenta así también la innovación en búsqueda de herramientas más eficaces de dinamización comercial sobre el territorio por eso

instamos al departamento de turismo comercio y consumo del gobierno vasco a analizar la propuesta de implantación de la denominación de tienda tradicional y tienda histórica junto con los agentes del sector en la comisión consultiva de comercio de euskadi que es el órgano consultivo adscrito a la dirección de comercio que tiene competencias

habíamos puesto en la enmienda la mesa de comercio pretendemos que sea el foro en el que debatir y consensuar los criterios de las ayudas que se implanten para fomentar el pequeño comercio y encontrándonos en un ámbito competencial propio

y si se logra en un órgano adscrito a la dirección de comercio un consenso y un acuerdo amplio en cuanto a la oportunidad y los criterios para el establecimiento de este tipo de denominaciones que pueden contar además con un especial apoyo o especiales ayudas específicas entendemos que la administración pública que el gobierno vasco y otras instituciones nunca pueden ni deben ser un obstáculo sino muy por el contrario agentes que promuevan e implanten con determinación

y las ayudas correspondientes también instamos en nuestra enmienda a que el departamento trabaje y consensue con los agentes del sector y en el ámbito de sus competencias los criterios sobre horarios y establecimientos de periodos de rebajas

se puedan adoptar las medidas más beneficiosas para el comercio en euskadi permitiendo además una efectiva conciliación y condiciones laborales dignas a las personas trabajadoras del sector comercial y proponemos este compromiso del gobierno vasco

de la forma más beneficiosa que el propio sector sea capaz de consensuar y de acordar porque no adoptar como dice bildu medidas invasivas en el ámbito del comercio anulando las adoptadas con anterioridad como por ejemplo abrir en días festivos supone supone cometer

al no asumir la sentencia del tribunal constitucional que declaró nulo el recurso de inconstitucionalidad planteado por el gobierno vasco allá por el año dos mil trece y se basaba dicho recurso en que el real decreto ley

de la competitividad invadía competencias propias del gobierno de euskadi que hacia un daño enorme a la mayor parte del tejido comercial vasco pero se hacía entonces se hacía este recurso y se planteaban una serie de medidas que paliasen ese daño al tejido comercial que se producía por el real decreto porque entonces se interponía el recurso y hasta que no saliera la sentencia era posible aplicar esas medidas cosa que ahora no

no es posible saltarse a la torera medidas por muy invasivas que nos parezcan

en junio del dos mil dieciséis salió aquella sentencia del tribunal constitucional que señalaba conforme a derecho comunitario tanto el artículo veintisiete como el artículo veintiocho del real decreto ley y por lo tanto no podemos cometer ilegalidades

por tanto por mucho que nos opongamos a la liberalización a la desregulación que plantea ese real decreto no cabe más remedio que asumirlo y en todo caso generar una serie de medidas a través del consenso con el propio sector que nos permita al gobierno vasco hablar con el gobierno de españa y tratar de reconducir dicho real decreto de la forma más beneficiosa para el comercio vasco y respecto al tema de los presupuestos

el incremento de los presupuestos sea equivalente a la media en la que se incremente el presupuesto del departamento en su conjunto lo que no resulta muy coherente señor casanova es que aquí pidamos ahora una proporcionalidad entre el peso del comercio en el producto interior bruto vasco y ese incremento en los presupuestos cuando luego venimos aquí

y ustedes no aprueban los presupuestos no apoyan los presupuestos del gobierno vasco

veinticinco treinta cuarenta cincuenta o un cien por ciento dichos presupuestos consejos vendo para mí no tengo y la realidad a veces nos da golpes como estos ustedes no apoyaron intentaron una negociación que por cierto en la cual no había

para el comercio vasco sí para otros asuntos pero ni una sola línea para el comercio vasco ese que ustedes ven tan en peligro y que nosotros compartimos que hay una preocupación que debemos atajar con medidas como está haciendo el gobierno nada más y gracias

datu batzuk eta zuzenak dira baina gaude hemen euskal herrian por encima de la media de la densidad comercial estatal y europea y teniendo en cuenta dónde estamos y cómo estamos tenemos que ser conscientes de que

y eso es una realidad que la tenemos que asumir no aceptar pero sí asumir porque las cosas van un poco por ahí no es un simple proceso de reconversión no es simplemente preocupación es una profunda transformación del sector comercial

como un alto grado de envejecimiento la edad media del sector está cerca de los cincuenta años con un treinta por ciento que supera los cincuenta y cuatro una reducida dimensión empresarial cambios tecnológicos

también los nuevos entornos de competencia global que obligan a gestionar que se estrechan cada vez más para el negocio y en tercer lugar y no menos importante las nuevas tendencias sociales y de comportamientos del consumidor que es la clave esa es la clave ligada a los otros dos factores que acabo de citar porque efectivamente los sueldos bajos pues también influyen lo ha visto y lo ha padecido el comercio de estos últimos ocho nueve años producto de la crisis efectivamente el consumo ha bajado y a partir de ahí el comercio

notado también todos los aspectos ligados a la liberalización pero si no ponemos el acento y la importancia si no somos conscientes

vinculado a los nuevos comportamientos de los consumidores nos estaremos engañando y estaremos engañando al sector pero creo que el sector es bastante consciente

y creemos que hay que desarrollar una determinada estrategia ayudada por las administraciones públicas al pequeño comercio

que todos esos factores y el factor ese fundamental que acabo de citar pueda ser utilizado en favor del pequeño comercio puede parecer algo muy complicado o casi imposible pero tenemos que

es digitalizar el comercio tradicional si se me permite una expresión

resumir todo lo que estoy diciendo y la acción pública pues efectivamente tiene que ir por la modernización y rejuvenecimiento del sector impulsar eso también tiene que ir por impulsar la competitividad empresarial

con no solo un nuevo comercio sino mejor comercio más rentables más satisfactorios más centrados en las personas más sostenibles etcétera etcétera tercer vector profundizar en la gestión comercial de los entornos urbanos

cuarto vector mejorar la eficacia de las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público en su diseño aplicación y seguimiento

disponibles y su coordinación con el sector y el tejido asociativo

que tiene yo creo que una visión más completa y más global

usted nos ha presentado sin pretender descalificarla que creo que tiene una visión un tanto reducida de toda la problemática que tiene el sector pues bien todas estas estrategias las tiene asimiladas asumidas y las está desarrollando el gobierno vasco y a partir de ahí creo que en mi opinión y en la opinión de mi grupo es un enfoque correcto adecuado que siempre junto con el tejido asociativo y el sector debemos de tratar de impulsar para alcanzar los objetivos que nos tenemos fijados

en el diagnóstico nosotros coincidimos es decir todas esas medidas liberalizadoras pues nosotros no estamos de acuerdo evidentemente con los festivos

pero sobre todo lo que abogamos y cataluña es un ejemplo lo que abogamos es por un acuerdo entre las administraciones y el propio sector para

y con los periodos de promociones o de rebajas porque como ha dicho la señora corcuera el gobierno vasco

de todas maneras seguimos pensando que tiene que haber un mínimo de flexibilidad por parte también de los sindicatos para intentar alcanzar un acuerdo en estas materias y ya para finalizar

el tema presupuestario bueno señor casanova no es el momento no es el momento

sí que le pedimos un poquito de coherencia el momento será en octubre cuando este gobierno presente su proyecto de presupuestos de cara al año dos mil veinte

en la discusión para los presupuestos de este año que al final no salieron adelante

este gobierno ha diseñado unos presupuestos en el ámbito del comercio

en relación años anteriores y eso era algo reconocido por el propio sector sin embargo ustedes votaron en contra votaron en contra y aquí viene la segunda pata de la petición de coherencia que le hago yo

proponer en el ámbito de las competencias o de los temas de los cuales es responsable en el seno de su grupo parlamentario

y en este caso medidas de incremento presupuestario pero primero lo tendrá que negociar con su propio grupo parlamentario porque el señor otero puede que venga y le diga

impulsar las energías renovables y la señora ubera puede pretender más dinero para el ámbito de la sanidad y el ámbito educativo y la señora etxebarrieta

primero coherencia para negociar en el seno de su grupo parlamentario sin con este tipo de propuestas provocar

que no responde creo yo a la realidad y los presupuestos a discutirlos en su momento eskerrik asko eskerrik asko uribe etxebarria jauna

de la asociación efectivamente hablamos de comercio el grupo eh bildu nos presenta una iniciativa por la que dice la iniciativa que se insta al gobierno a tomar medidas

para el impulso del pequeño comercio medidas de choque medidas de urgencia y las medidas que ya se han dicho aquí pero que las voy a volver

en una mesa de diálogo con las diputaciones oiga de urgentes esto poco

con mucho empeño pues a finales de año por lo tanto no es una medida de choque no es una medida de urgencia es una medida

podemos contribuir a que se aplique y como

la urgencia creo que es más de bildu de usted que de la urgencia que esta medida tiene la virtualidad de aplicarse inmediatamente habla de crear denominaciones de tienda tradicional y tienda histórica y darles ayudas reconocimiento y promoción

tampoco se puede hacer de manera urgente no se puede aplicar mañana esto habrá que hacer un decreto incorporarlo en alguna medida efectivamente en un plan de ayudas sí pero urgente no no se puede y luego ya la tercera era

esto se puede articular con mucho cuidado algunas cosas ya hay comercios que lo están aplicando y nadie por ejemplo hay farmacias abiertas casi ya doce horas catorce horas y nadie va a protestar a sus puertas

que sí que estén abiertos mucho mejor y otros comercios que no

y por último hablaba usted de los presupuestos aumentar un veinticinco por ciento los presupuestos hombre en algunas partidas en otras no

en el dos mil dieciocho en el dos mil diecisiete y hemos aumentado en total en el sector del comercio un dieciséis coma seis por ciento y muy bien

y luego que el gobierno las ejecute que es donde también fallamos bastante de manera reiterativa pero es que señor casanova usted ha planteado esto en un contexto donde tenemos pendiente un debate monográfico del sector del comercio y por lo tanto

nosotros nos vamos a abstener ante estas medidas que usted nos plantea por qué

mucho más precisa en aquellos aspectos que usted aquí reseña de manera bueno pues así como unas pinceladas pero yo creo que un monográfico

espacios del sector del comercio y podemos incidir en medidas que

por eso le decía que me parece que la urgencia ninguna de las medidas se puede aplicar de manera inmediata requieren de un trabajo previo importante

es una traer un debate hoy aquí porque a usted le interesaba

no será igual casualidad porque estamos en periodo electoral igual digo se me ocurre y señor casanova efectivamente llevamos esta legislatura de manera

atraviesa el sector del comercio minorista todo lo que usted ha dicho aquí para justificar y que también otros miembros de esta cámara de los grupos que han intervenido pues ya lo hemos dicho y que efectivamente

importantes el comercio minorista debe de adaptar su forma de comunicar con el cliente y cómo buscar ese método de conservar su identidad

y ese es un reto que no baladí y que es complicado

seguir siendo ese espacio cerrado con baldas y con productos allí colocados pues tiene que hacer un tránsito efectivamente

el cliente qué busca hoy la información está en la red información de un producto ya lo tenemos por qué vamos al comercio porque lo queremos ver lo queremos tocar queremos darle la vuelta mirarle por abajo y por arriba quiero verificar que lo que me están diciendo es verdad y

el comercio pues que el cliente compre en su tienda y para eso qué tiene que tener

cualificado que sepa aportar a ese producto un valor añadido

y todo esto efectivamente pues lo podemos desarrollar

en un pleno monográfico y estructurar medidas que ayuden al comercio a adaptarse a esta nueva realidad que no

fácil pero no se puede ejecutar de manera fácil y es que es una realidad paradójicamente en esta era que estamos en la era digital que compramos muchos por pero también se impone como les decía el marketing basado en los sentidos en el tocar en el ver en el apreciar en el probar

ropa deportiva que meten un gimnasio dentro de su tienda para que se vea cómo se activa esta máquina cómo funciona cómo no

cómo lo traemos a nuestro espacio pues ahí es donde tendremos que

y contribuir a que el comercio pueda ir aplicando técnicas el cliente busca y que no las tenemos desarrolladas nosotros encantados de contribuir

pero señor casanova se ha equivocado esto lo haremos dentro de un mes en un debate monográfico

esto no era no nos aporta nada es enredar en algo que yo creo que va a tener mucho más fundamento en un debate monográfico que en el día de hoy

es delicada y no atraviesa por su mejor momento desde elkarrekin podemos entendemos la importancia que tiene el pequeño comercio como dinamizador de la economía local

este tipo de comercio como uno de los pilares de un modelo de ciudad más sostenible

barrios y municipios en la actualidad en el sector comercial vasco se está dibujando un escenario donde se cierran los pequeños establecimientos individuales

y donde el número de establecimientos comerciales se ha reducido y aumenta el empleo básicamente a través de asalariadas y asalariados de las grandes cadenas comerciales multinacionales y esto no es un empleo de calidad

así como un comercio digital

que crece de forma exponencial afecta directamente al pequeño comercio vasco hasta el punto de que la pérdida de empleo en el pequeño comercio en su mayoría regentado por autónomas mediante autoempleo pone de manifiesto

que es necesario recuperar el modelo de emprendimiento y el modelo que fortalece al pequeño comercio y al comercio local esta evolución ha hecho que por ejemplo euskadi haya pasado de ser el territorio del estado con un mayor número de emprendedores a estar quedándose a la cola a nivel estatal según además las estimaciones de euskomer ha perdido unos cinco mil comerciantes autónomos en los últimos diez años

la paradoja de que el empleo en el comercio minorista vasco

mientras que el cierre de establecimientos principalmente en las zonas rurales también aumentó un dos por ciento

en el sector del comercio vasco no se tiene en cuenta la perdida de las trabajadoras autónomas que son quienes regentan prácticamente la mitad del tejido comercial en euskadi el pequeño comercio

y los centros comerciales muchos son los que no están pudiendo con esta presión y acaban cerrando somos muy conscientes de que el ritmo de vida los horarios y sobre todo la comodidad

donde lo podemos encontrar todo de diez a diez y hacerlo más ágilmente

y nosotras llevamos tiempo reflexionando sobre lo que aporta

para fomentar el consumo en las tiendas de barrio es imprescindible reforzar el comercio local porque entendemos que ayuda a nuestras vecinas tanto a las propietarias como al personal empleado en esos comercios los que son normalmente

con el propio barrio algunas de ellas lo son además desde varias generaciones

que tenemos cerca y a la que nos encontraremos en el día a día a nada que el pequeño comercio funcione repercutirá en nosotros porque el bienestar de quien está a nuestro alrededor favorecerá la creación de empleo

habrá que relevarles cuando se jubilen etcétera consumir en los comercios de proximidad y fortalecer la economía local es una buena fórmula para jerarquizar y priorizar actuaciones y contribuir a la vez a la recuperación de los mismos esto ocurre porque el dinero que invirtamos en las tiendas de nuestro barrio sigue circulando por el mismo

próximo hay estudios que demuestran que el dinero gastado en comercios de proximidad circula en el barrio tres veces antes que desaparecer en la económica general este beneficio revertirá en nuestro favor

no a grandes empresas nuestro estado de bienestar y calidad de vida crecerá de forma sustancial al activar el consumo

es invertir en uno mismo así que en este sentido los comercios locales entendemos que animan la vida cotidiana del barrio dan ambiente y personalidad a las calles y

convirtiendo estas calles y barrios en zonas transitadas y de esta forma contribuyendo

de los propios cascos históricos una pequeña empresa

de sus responsables y de quienes se esforzaron por construirla sacarla adelante y atenderla y muchas de ellas como ya he dicho han ido pasando de generaciones en generación y han crecido

el oficio específico no deja de ser opcional pero desde nuestro punto de vista merece la pena apoyar a gente que arriesga y emprende la aventura que supone abrir un negocio poniendo en el mucho tiempo esfuerzo

generacional y contribuir al mantenimiento de los establecimientos de toda la vida el comercio local es un auténtico motor de consumo de productos locales y fabricados en la zona nos está empezando a sorprender el hecho de que los tomates

y es esta línea la que entendemos que tenemos que seguir además nos posibilita conectar con los ciclos de la naturaleza al consumir productos de temporada

fresca y de la época en la que estamos a la vez que apoyamos a las agricultoras y productoras locales

es la confianza y el trato personalizado detrás del mostrador nos encontramos un auténtico una auténtica especialista

aportan un valor añadido al simple acto de comprar esta misma política de exclusividad hace además que la mayoría de los casos

y los comerciantes nos faciliten todo cuanto esté en su mano para que salgamos de su establecimiento con ganas de volver esta forma de consumo hace además que compremos por decisión propia lo que necesitamos

de productos que nos entran por los ojos en esas estanterías de diseño y tan estudiadamente colocadas

los comerciantes locales tienen que competir no solo por precio sino por oferta de ocio

superficies en estos días en que vemos en los medios de comunicación

los pequeños comercios son los grandes perjudicados a la vez que los grandes olvidados

es un menor precio en los productos que nos venden pero nos hemos preguntado alguna vez cómo logran obtener los beneficios a la vez que reducen los precios

de ética empresarial para reducir costes las grandes superficies escondes unas condiciones de trabajo deficientes

una explotación a productores y agricultores a los que obligan a vender por debajo del coste de producción promoviendo la deslocalización de las empresas llevando acabo sino de forma directa

en la mayoría de los casos de países subdesarrollados y que están dispuestos hacerlo y maximiza los beneficios de muchas

en estos casos nos ahorramos unos euros en la compra pero nos repercuten costes indirectos que asumimos sin darnos cuenta como pagar el coche la gasolina el parking las bolsas

agobiados por llegar a fin de mes y con un menor margen para bajar los precios las administraciones debemos ser conscientes de la necesidad de fomentar

la existencia de la pequeña empresa que vemos en el más modesto negocio comercial familiar además es innegable que existe una pasividad por parte de las administraciones hacia el pequeño comercio

que les posibiliten competir en el mercado en igualdad de condiciones con las grandes superficies medidas que regulen cuestiones

las condiciones económicas con los proveedores las normativas higiénico sanitarias la financiación las ayudas y subvenciones para el desarrollo de actividades y oficios tradicionales a punto de desaparecer

unas medidas que consoliden y fortalezcan el tejido comercial en euskadi y que tengan en cuenta el importante papel económico y social que desempeña el pequeño comercio

una elección quizá más profunda de lo que nos hayamos parado a pensar utilizar el comercio de proximidad o de barrio implica mantener vivas las calles en consecuencia son más seguras más habitables un escaparate encendido y una tienda abierta en horario comercial hace que la calle sea mucho más atractiva

las luces de los comercios mantengan un grado de actividad que favorezca la relación social y la vida en las calles por lo tanto nosotras estamos de acuerdo

con respecto al comercio local y de proximidad que se encuentra en una situación complicada y es necesario que se tomen medidas concretas que ayuden a su fortalecimiento y dinamización tal y como plantea hoy el señor casanova y por ello nosotras desde elkarrekin podemos

en el marco de un pleno monográfico específico donde se adopten resoluciones y acuerdos

del pequeño comercio en euskadi un trabajo amplio y riguroso que no se quede

con una batería de propuestas a modo de parche deprisa y corriendo y sí

y llevamos defendiendo desde que entramos en esta institución no una iniciativa en periodo preelectoral que solo responde a los intereses partidistas y a la búsqueda del relato mediático

del monográfico que usted mismo realizó y que se producirá esperemos

en no más tardar del próximo mes y que además este pleno sí da cabida a que

en lo que se refiere a lo local por ello nos vamos a abstener porque no entendemos las prisas y las urgencias ahora porque entendemos que es necesario

no que sean un simple parche cuando en junio podremos dar respuesta a los múltiples factores que están poniendo

llegando a acuerdos y concretando y abordando las soluciones y medidas a tomar de forma más específica y es ahí

en cuestiones con las que están a favor porque no les gusta el momento en que está planteado mire este grupo euskal herria bildu en el ámbito del comercio desde el tema del

la nueva ley de actividad comercial la convocatoria del pleno

está trabajando de forma continuada en el ámbito del comercio se puede decir que es electoralista quien aparece solo en determinados periodos este grupo es el que está realizando una actitud sostenida en defensa del pequeño comercio

de forma continuada otros y otras parece ser que votan en función del momento en el que nos encontremos y es verdad como decía el señor uribe etxebarria que esto no es un plan estratégico de reactivación del pequeño comercio ni lo es ni lo pretende ser ni se oculta bajo una denominación

la urgencia mire titulares como este triste adiós de firmas legendarias tiendas tradicionales comercio tradicional pequeño comercio con un impacto emocional incluso importante en nuestras vidas que desaparece y que se cierra día a día

de si las dejamos para un tiempo posterior e indefinido

de euskal herria bildu el que ha tenido la iniciativa de convocarlo pero estamos hablando hoy de fiscalidad de horarios de rebajas de tiendas tradicionales de presupuestos de más recursos para el sector del ámbito competencial hombre no es ni pretende ser un plan estratégico pero sí que pone

son fundamentales y aunque no vayan a salir aprobadas nosotros nos congratulamos de que esta cuestión entre y de forma irreversible en el debate político y un estatus de centralidad por su dimensión como decíamos antes

cualitativa muchas veces cuando nos encontramos en periodo de presupuestos vamos a hablar de presupuestos y en el departamento de desarrollo económico se habla también de agricultura y hablo con mi compañero que lleva también estos temas y décimos hombre en agricultura más dinero no se puede pedir

y se dedican ciento y pico millónes de euros por qué pues porque la agricultura aporta cosas más allá

lo conocerán perfectamente articula el territorio es depositaria de una

preferencial el sector del comercio ni siquiera estamos pidiendo eso ni siquiera estamos pidiendo un plus

la asignación presupuestaria al peso que tiene la economía independientemente de que además de su actividad comercial y de su actividad económica aporta a las ciudades vertebra las ciudades a las ciudades y estamos pidiendo no una solución puntual estamos pidiendo que se emprenda el camino hacia esa proporcionalidad y estamos proponiendo un acuerdo como por ejemplo al que se ha llegado aquí

anual de un cinco por ciento y que trasciende los acuerdos presupuestarios y trasciende los gobiernos es una decisión de país

un camino hacia la equiparación y hacia el reconocimiento del papel económico y social que tiene el comercio en el ámbito presupuestario

en el punto tercero decía la señora corcuera que no podemos desoír determinadas

pedimos al gobierno en el original decía al gobierno central al gobierno central

aunque sean legal los decretos establecidos pero el propio gobierno puede hacer otros decretos o puede abstenerse de legislar en el ámbito del comercio y este parlamento se lo puede pedir como le ha pedido por ejemplo que

le ha llevado a error esa cuestión de la traducción

yo creo que de la misma forma que en otros ámbitos culturales sociales y económicos tenemos especificadas aquí hay que pelear por la defensa del pequeño comercio

también las costumbres las formas de vida son distintas y por tanto tenemos que mantener el sector del pequeño comercio

la desaparición de los grandes centros comerciales nadie propone la desaparición del comercio electrónico

que los retos no solo pasan por los puntos que hoy hemos traído a discutir y reitero que ha sido este grupo

para poder hacer un pleno monográfico y entrar con la debida profundidad pero también pasa por estas cuestiones también pasa por cuestiones que son de urgencia y también pasa por cuestiones que si hubiera habido voluntad y es verdad que ni los tiempo electorales

por los que hemos pasado han propiciado un diálogo constructivo para poder llegar a un acuerdo pero estoy convencido de que por lo menos a partir de hoy esta cuestión el tema de la defensa del pequeño comercio

en el debate político y fruto de ello cada vez se van a tomar decisiones

por una cuestión fundamental porque hay cosas que son insostenibles y es insostenible la falta de atención la falta de dedicación y la falta de recursos que este sector recibe por parte de las administraciones

quizás no hoy pero en momentos posteriores y más oportunos
podamos emprender ese camino eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

mire señor casanova se sigue empeñando usted en hacer demagogia hablando

ante la falta de atención del departamento con respecto al pequeño comercio y nada más incierto

hay una interlocución constante con el sector por lo tanto nada de falta de atención a usted le gustará más le gustará menos y en periodo electoral seguro que no nos gusta nada ni por asomo ni llegar a consensos no quita para que la realidad sea que el departamento de comercio se dedica a atender al comercio a todos los operadores del comercio a todos los operadores del comercio

en todo lo que es la operación del sector del comercio

insistiendo porque el gran adversario del comercio tradicional del pequeño comercio está fuera de nuestras fronteras

enfoque trasnacional y con un impulso de las instituciones europeas que son las que tienen en este sentido la capacidad de regular y las posibilidades

para conseguir que todos los operadores del comercio jueguen con las mismas reglas en la regulación de la fiscalidad como ya le he dicho antes hemos hecho una propuesta que a mí me parece que es sensata porque este tema hay que analizarlo no puede uno venir aquí a botepronto

así mismo porque tenemos competencias y podemos hacerlo cuando nos estamos dejando a los sectores transnacionales fuera del juego de la fiscalidad autonómica vasca pero también de poco sirve que el departamento de comercio apoye al tejido empresarial

o diversifique la oferta o regule y realice campañas de sensibilización si luego la persona consumidora y usuaria decide banalizar su compra ir a precio y no fomenta con sus hábitos la sostenibilidad y la creación

nuestros pueblos y ciudades porque no olvidemos que esa es una de las claves de funciones que tiene también y que aporta el comercio vasco como algunos de ustedes han señalado

en este caso la fiscalidad de todo el comercio teniendo en cuenta todo el ámbito en el que opera el comercio nosotros sí creemos que el gobierno vasco debe de seguir en la tarea que tiene encomendada desde el inicio de legislatura

a través del refuerzo de determinadas políticas programas ayudas subvenciones en fin promocionando los planes las propuestas que las propias federaciones y asociaciones

que hay un plan estratégico que hay un plan director de comercio y que todo es mejorable nada es absolutamente fijo hay

tanto del programa del plan estratégico como el plan director y seguramente se verán enriquecidos

monográfico de la iniciativa que planteó bildu pero lógicamente ni van a ser propuestas fijas para siempre sino que van a ir requiriendo

se ha propuesto desde el inicio de la legislatura fomentar como digo de común acuerdo con las asociaciones y las federaciones de comerciantes y por eso nuestra enmienda

era que hubiese un pacto y un consenso de cuáles son las medidas

que facilitan la tarea del pequeño comercio vasco para luego junto con las instituciones competentes como en el caso del gobierno de españa modificando y quitando regulaciones que efectivamente no son ventajosas

para el comercio en general porque no olvidemos que el real decreto ley de dos mil doce

presupuestaria y fomento de la competitividad no solamente atañía al comercio impulsaba y hacía verdaderas desgracias de muchos de los sectores productivos de la actividad económica no solamente de la comunidad autónoma vasca sino de todas las comunidades de españa por lo tanto intentemos que el nuevo gobierno que se forme a partir

pronto en unos meses pueda llevar a cabo esta modulación

francamente producen desventajas en este caso para el pequeño comercio pero el autogobierno efectivamente había un problema de traducción

más y mejor autogobierno siempre pero bajo el parámetro de la legalidad y lo digo porque como también en la ponencia de autogobierno

pues aprovecho el viaje y le digo que efectivamente para el caso del comercio

pero siempre bajo el paraguas de la legalidad y si la legalidad no atiende

modifiquemos la legalidad en los cauces que se nos prestan de las instituciones correspondientes nada más yo espero que realmente la enmienda nos parece que la que va a salir adelante por lo que han significado los grupos políticos yo creo que es una enmienda razonable pero además es que es una enmienda comprometida y de compromiso para el gobierno respecto al sector del pequeño comercio que creo que hoy algo
habrá ganado y seguro que algo ha ganado nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

es realismo y si no se hace un buen diagnóstico yo creo que se cae o se puede caer en el error de no implementar las medidas adecuadas así dicho en general y bueno la tendencia en un país abierto como euskadi en un mundo cada vez más abierto

y sobre todo y ante todo con las nuevas pautas de comportamiento de los consumidores que con un clic

pues da qué pensar haciendo un diagnóstico realista que la densidad comercial que la tenemos actualmente por encima de la media estatal y europea vaya a ir descendiendo lo cual no es resignación es hacer un diagnóstico y a partir de ahí pues bueno pues implementar efectivamente las medidas necesarias entre todos eskerrik asko

sí gracias señora presidenta si me permite desde el escaño porque creo que

en las políticas de apoyo al comercio pero señor casanova me habla de presupuesto mire nosotros hacemos enmiendas a los presupuestos todos los ejercicios todos los años unas veces los podemos incorporar y otras no pero desde luego no hemos fallado nunca y ya llevamos muchísimo tiempo

minorista nos hablaba de una decisión de país si algo ha contribuido también a que algunos establecimientos

y también el comercio se ha visto muy afectado es subir un veintidós por ciento del salario mínimo interprofesional

señor casanova y no se ha obligado ni a la formación ni a la profesionalidad ha sido tabla rasa y eso que ha afectado

de las pymes pues desde luego no está contribuyendo nada a que el comercio resurja por lo tanto también habría que darle vueltas a algunas decisiones que se toman así por decreto

creo que no le ha hecho ningún favor en este momento esa cuestión

vayamos a ese debate monográfico con muchas propuestas de todo ámbito y que el gobierno también se comprometa a ejecutar aquello que se acuerda en esta cámara

y las partidas presupuestarias que figuran en esas leyes nada más muchas gracias

aiara herri orozko arakaldo okondo

geográficos ni su orografía lo que le hace especial es esa relación esa convivencia que existen en este eskualde entre el sector primario

porque a pesar de que los ingresos económicos de la mayoría de los habitantes de estas tierras de euskal herria provengan del sector secundario todavía hoy subsisten explotaciones ganaderas y agrícolas que si bien

pues sí que es cierto que ayudan a mantener la esencia de lo que un día fue

el queso la miel y las vacas se fusionan a la perfección con las válvulas las soluciones tubulares los cruzamientos de vías o el vidrio y aun a riesgo de pecar de exceso de nostalgia podríamos decir que el fabián de mariaca

veintiuno divisaría desde su torre el trajín de los relevos de tubos reunidos o que cada vez las menos numerosas abejas que transitan por la sierra salvada con sus idas y venidas son a día de hoy testigos de las coladas de tubacex

esquivan en su fusión con la naturaleza el recorrido de los camiones que diariamente transitan por la amenos seiscientos veinticuatro

encarguémonos de que esta convivencia perdure avance se modernice y no muera

kider traner somolsa lau urduñakoa

no han sido la única fuente de destrucción de empleo o de precariedad e incertidumbre entre la ciudadanía

y sigue generando frustración por la incapacidad existente a la hora de crear empleo y muestra de ello es el último ejemplo que acabamos de poner

otro de los motivos que ha originado la destrucción de empleo es la llegada de capital de algunos grupos financieros ajenos a la comarca grupos financieros sin arraigo sin apego alguno a la zona que no dudan

trabajadoras de las empresas que apadrinan en cuanto tienen el menor de los problemas y en el eskualde tenemos dos ejemplos muy claros sobre lo que acabo de decir mubea y nausa a día de hoy en manos de un financiero entre otros

o la antigua ituarte qué poco queda de aquella ituarte la de los inicios

la mayor parte de la empresa que a día de hoy se llama valvospain está en manos de diferentes grupos financieros

a la grave crisis que atraviesan más de ciento veinte trabajadores y trabajadoras que acumulan dos años de retrasos en sus nóminas y más de dos meses

personas familias que se enfrentan a un futuro laboral tremendamente incierto ante el que solo puede salir a la calle a concentrarse cada pocos días y no les queda otra

de trabajo mirar al techo mirar al cielo y ver

de tubos reunidos llevan sufriendo unos cuantos durante los últimos años

gestión económica más de mil empleado y empleadas que han sido abocados a una situación de desempleo intermitente alegando motivos no productivos

sometidos también hay que decirlo a un mínimo control o seguimiento por parte de quienes los conceden es más hay uno de ellos incluso

mi intervención he hecho referencia a puestos de trabajo no podemos olvidar que detrás de esos puestos de trabajo de un puesto de trabajo no solamente hay

hay familias familias que dependen a veces de ese único salario o que este también se hace

más de un ingreso muchas veces esos ingresos provienen de salarios precarios no olvidemos que a día de hoy la empleabilidad no es sinónimo de bienestar porque existen muchos y muchas trabajadoras pobres

aldizkakorik hemos intentado visualizar la situación económica

hemos hablado sobre sus consecuencias y ahora toca buscar soluciones y por eso eh bildu vuelve a poner sobre la mesa en esta cámara

consideramos que es urgente crear una ponencia que analice junto a diferentes agentes sociales económicos y sindicales la situación socio económica de esta comarca en aras de buscar soluciones y reconducir esta terrible tendencia

al desempleo a la deslocalización de empresas a la falta de inversión y a la pérdida de arraigo

lana es necesario elaborar un plan de choque con medidas inmediatas que frenen la deriva socio económica de la comarca

un plan estratégico que apueste por un modelo económico

adaptado a los tiempos adaptado al siglo veintiuno y estas propuesta son tanto las que eh bildu como los grupos que sustentan

reflejar en nuestra enmienda de transacción ha sido fácil llegar a un acuerdo tengo que decirlo porque desde el primer momento ha habido voluntad negociadora

de los grupos como grupos no enmendantes pues aprueben esta enmienda por unanimidad y en ese acuerdo que tienen ante ustedes reflejamos la necesidad de esforzarse y comprometerse de manera multilateral para revertir esta situación proponemos la creación de esa ponencia que además de abordar

tenga en cuenta también el desarrollo de los sectores primarios y de servicios esta última parte cobra especial relevancia en nuestra comarca como he intentado al inicio de nuestra intervención y por último buscamos soluciones soluciones que derivarán de ese análisis previo y que desembocarán en un plan interinstitucional acordado con las instituciones y con los agentes implicados en esa comarca esperemos

porque a día de hoy lo sigue siendo en muchos sentidos esperemos que el resultado de esta ponencia no se demore tanto en el tiempo como las décadas de inmovilismo que todavía hoy se sufren ante la construcción por ejemplo

o ante la construcción de las depuradoras de markijana y basaurbe eta eskualde berezi hau ahaztuta

sí gracias presidenta buenos días otra vez y bienvenidos

y los problemas de la comarca de aiara aunque no estábamos de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se hacían en la proposición no de ley ni con las comparaciones que se realizaban

por eso mostramos nuestra satisfacción por el acuerdo logrado con la proponente de la iniciativa los socialistas vascos en diversas ocasiones hemos hecho llamamientos a las instituciones

poner el foco en la necesidad de un impulso de la diputación foral de álava y también de un acuerdo político interinstitucional para la recuperación de la comarca de ayala como referente

con esfuerzo y tenacidad también importantes acciones que sin duda han tenido efectos positivos aunque también sin duda queda trabajo y tarea por hacer las reivindicaciones de las personas que viven y trabajan en la comarca de ayala

que ahora acaba para los socialistas por ejemplo era necesario un plan de infraestructuras básicas que contemplase actuaciones en los colectores y en la depuradora del nervión las mejoras en los centros de mayores la recuperación

la mejora de infraestructuras deportivas como el polideportivo de llodio se hacía necesario un plan de movilidad en el que se priorizase la mejora del transporte público de los municipios de la comarca con gasteiz además del intercomarcal y que mejorase la conectividad con los hospitales de bizkaia también la accesibilidad a barrios y zonas así como a infraestructuras públicas que planteaban una accesibilidad compleja

y también se ha planteado por los socialistas vascos un plan de reactivación económica en el que a través del consenso con los agentes económicos y sociales y con las propias instituciones vascas se procurasen entre otras medidas inversiones en el matadero municipal de llodio la potenciación de la actividad forestal para el uso energético industrial

los municipios ayaleses como espacios de especial atractivo comercial y turístico trabajando también el ámbito del sector primario de forma conjunta con el turismo llegando incluso a promocionar la ruta del txakoli con determinación en la línea del acuerdo adoptado

entre instituciones bodegas y empresas a las que se han sumado las localidades vizcaínas

una iniciativa que se pone en marcha después de que la entidad comarcal haya asumido la gestión del turismo en ayala tras la disolución de la sociedad

en la que estaban integradas empresas privadas y entidades públicas y con ese mismo espíritu pero con la gestión centralizada en la cuadrilla se ha asumido la difusión de la riqueza gastronómica y paisajística de la comarca

con trabajos de participación comunitaria el proceso participativo de la cuadrilla de aiara para un futuro sostenible

ha contado también con un plan de sostenibilidad para el periodo dos mil diez dos mil dieciséis ha contado con un plan estratégico dos mil diez dos mil dieciséis

a dos mil veinticinco que culminó con un plan de acciones estratégicas a dos mil veinticinco es decir una serie de trabajos de reflexiones de puestas en común en los que participaron económicamente tanto la diputación foral de álava como la propia

y de aquellos trabajos se han derivado actuaciones e intervenciones interinstitucionales que han hecho posible que la cuadrilla

más altos de su historia tanto en lo que se refiere al ámbito

así las intervenciones públicas se han centrado en la promoción del empleo en el impulso de iniciativas empresariales en promover ayudas en materia comercial

el mejorar las infraestructuras de abastecimiento de agua y servicios entre otros asuntos

y por tanto como comarca aiara podrá tener problemas sin duda

ante la iniciativa de bildu pero no podíamos considerarla

desfavorecido en términos de lo que la unión europea considera zonas desfavorecidas unos indicadores que sí eran de aplicación hace un tiempo

para formar y conformar la ponencia que trató

a la comarca de aiara porque no estaban en los mismos términos considerados por la unión europea indicadores de pobreza de paro de producto interior bruto son datos que la propia unión europea utiliza para incluir esos ámbitos denominados como zonas desfavorecidas y poder promover ayudas y fondos europeos a la regeneración económica y social también de las zonas sobre las que actúa

de la comarca de aiara que como digo no deja de tener problemas pero no podíamos equiparar simultáneamente lo que ha sido la ponencia de la comarca de ezkerraldea de meatzaldea y de oarsoaldea los problemas que tiene la comarca de aiara y los municipios

y satisfactoriamente además de acuerdo en la enmienda transada con euskal herria bildu una enmienda que recoge también que hacíamos nosotros los socialistas vascos y nacionalistas vascos de constitución de una ponencia para estudiar

de orduña de orozco de arrankudiaga y de arakaldo

se abordara la actual situación socioeconómica para proponer acciones que promoviesen la diversificación económica la evolución del tejido industrial hacia el formato de la industria cuatro punto cero y el desarrollo de los sectores y de servicio y además creemos que son necesarias medidas que impulsen la modernización de las actuales

las líneas los objetivos los criterios necesarios

de la comarca ampliamente consensuado entre las instituciones para que pueda desarrollarse con ellas con los agentes de la comarca y con todos aquellos operadores

siguiendo las pautas de lo acontecido en la ponencia de análisis de la situación

una serie como digo de resoluciones que promuevan esa regeneración económica y social

y por eso bajo otros parámetros definitorios de la situación

al envejecimiento de la población de esa comarca la falta de población joven o el escaso poder de atracción de la población desde otras comarcas y también desde la reflexión sobre la importancia o no de la pérdida de la superficie dedicada a la agricultura

en innovación es la adecuada y relacionando toda esa información atendiendo a la situación social y económica formativa de vivienda también de las zonas que tiene la comarca y los municipios aledaños en esa ponencia podremos proponer acciones a corto medio y largo plazo que sin duda van a redundar en beneficio de la propia comarca de los propios vecinos y beneficie

de esa propia comarca que yo espero que sea un futuro de verdad próspero porque en ello también nos vamos a empeñar
los socialistas vascos nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

eguerdi on sé que la cabra siempre tira al monte y por eso no voy a defraudar y comenzaré con una reflexión

de la comarca cantábrica alavesa y que dice respecto a los indicadores comarcales lo siguiente en cuanto a los datos económicos si bien la realidad municipal es muy diferente se puede decir que la comarca presenta unos datos de creación de empleo más positivos para casi todos los sectores

el sector con la evolución más positiva ha sido el primario aunque algo inferior a la evolución del territorio alavés en su conjunto seguida del terciario y los peores datos evolutivos

seguido del secundario y continua sin embargo la evolución del pib per capita es ciertamente negativa muy por encima del conjunto de araba

que creaban las empresas de la comarca en el dato de eustat dos mil quince el pib per capita de la comarca es del ciento cinco por ciento de la comunidad autónoma de euskadi

aunque inferior a la de rioja alavesa que era ciento setenta y seis por ciento

para darles una contextualización de qué comarca estamos hablando la tasa de paro

en euskadi ronda está un poco por debajo del diez por ciento pero para hacer comparativas se ha utilizado el formato utilizado por lanbide

sí nos permite hacer una comparativa así

habiendo bajado un uno coma dos por ciento en un año evolución por cierto positiva

según lanbide el índice de paro registrado en enero del dos mil diecinueve hace cuatro meses

un diez por ciento es decir todos estos datos pesados coñazo todos estos porcentajes más o menos próximos a una realidad

puede presentar algunos datos superiores en cuanto a paro respecto a euskadi datos en ningún caso espectaculares como para reseñar como notablemente diferenciados

está en una posición intermedia es decir la producción es equilibrada

todo esto no es para terminar por decir que no hace falta trabajar para mejorar esos datos para nada y que no hace falta un trabajo en ponencia específico de la comarca

simplemente es para contextualizar una realidad que siendo algo diferencial respecto a la media de euskadi no deberíamos considerarlo necesariamente como alarmante puede que preocupante aunque menos sobre todo viendo que variables macroeconómicas tienden poco a poco a restaurarse es cierto que la crisis económica del dos mil ocho

y que le está costando recuperarse más que a otras zonas lo que le coloca en una situación delicada frente a posibles nuevas embestidas de la economía por todo ello y entendiendo que en casos mucho más delicados como ezkeraldea y oiarsoaldea fue posible hacer

permitió finalizarla con acuerdos unánimes que a su vez han permitido a las administraciones establecer un plan de apoyo

que permita hacer algo similar para poder poner en marcha un plan que ayude en la medida de lo posible a acelerar los cambios hacía la mejora

independientemente de que cada municipio tiene unas tasas macroeconómicas bastante diferentes la comarca depende como hay otros casos en euskadi

y una gripe de cualquiera de ellas es una neumonía para la comarca y eso realmente es un riesgo pero independientemente de que hagamos una ponencia

así según constata eustat en dos mil quince el porcentaje de empresas

por cierto la más alta de euskadi por delante del duranguesado con el cuarenta y uno cuando la media en euskadi era del treinta y siete coma dos

el dato y ahora es del treinta y nueve coma cinco por ciento algo más baja pero todavía situada en el tercer lugar en el ranking de euskadi es decir estamos hablando de una comarca

destacada respecto a euskadi todo ha descendido algo pero no se trata insisto al menos en lo que a innovación se refiere de una comarca con necesidades

un desarrollo más acelerado de la comarca ha logrado introducir

lo cual va a suponer seguramente muchas más ayudas

del municipio a la vez que ya lleva trabajando desde hace tiempo en la formación profesional dual tanto con tubacex como con tubos reunidos sin olvidar

y a los cuantiosos proyectos apoyados desde el área de desarrollo rural aunque siempre los datos que utilizamos se refieren generalmente a la industria nuestra enmienda ha pretendido proponer que se aborde de un modo global la realidad socio económica de la zona es lo que hemos aportado nosotros desde nuestra enmienda

un programa de aceleración de la recuperación más global es decir una comarca a la que le está costando algo más recuperarse de la crisis pasada pero que está haciendo un trabajo para es una comarca viva con capacidades propias y espero nuestro grupo espera

en acelerar ese proceso que debe surgir más internamente que otra cosa y la transacción

porque a nosotros nos parecía absolutamente normal bien incluso o muy bien acotar una zona de euskadi con algunos problemas específicos

para trabajarla conjuntamente con agentes institucionales y sociales

y con esas conclusiones concretas poder abordar un programa por eso

gracias señora presidenta señores consejeros señorías el grupo parlamentario eh bildu propone constituir una ponencia para analizar la situación socio económica de las comarcas de aiara y nerbioi

vamos a votar a favor desde el primer momento tuvimos claro que nos parecía muy interesante una ponencia sobre esta comarca

un programa de ponencias para distintas zonas de euskadi para que las conozcamos para que no vengan aquí solo cuando tienen problemas sino para conocer los potenciales de cada comarca

desde el primer momento estábamos a favor de esta ponencia el argumento para justificar la ponencia se basaba en tres aspectos la tasa de paro

que superaban el trece por ciento hablaba de la despoblación y también de la amenaza de la deslocalización de empresas que es permanente

y si nos fijamos en amurrio pues en este momento estamos en un paro del catorce coma cinco por ciento en marzo del dos mil diecinueve

estábamos en un diecisiete por ciento y señora blanco usted era parlamentaria en esa legislatura y no le pareció no le llamó la atención el paro del diecisiete por ciento yo le puedo decir que la población activa en amurrio del año dos mil siete

ha aumentado un diecisiete por ciento en los últimos diez años pero es que la población total la población total ha aumentado un cuatro coma siete por ciento

y la población activa que usted me ponía cara rara que es lo que me dice lanbide y le creeremos a lanbide

ha crecido si vamos a llodio nos fijamos también

la tasa de paro en llodio era el diecinueve coma nueve por ciento diecinueve coma nueve por ciento

oportuno convocar una ponencia lo digo para que quede constancia no le digo

es así en dos mil dieciocho estamos en el trece coma nueve por ciento la población activa en la última década ha aumentado un trece coma uno por ciento

dieciocho mil cuatrocientos ahí lleva la última década

la tasa de paro en dos mil dieciocho es del ocho coma uno por ciento

la población activa en la última década también ha aumentado un dieciséis por ciento y la población total ha aumentado un once por ciento

tasa de paro dos mil dieciocho diez coma tres por ciento dos mil doce catorce coma uno por ciento tampoco les llamó la atención

un dieciocho por ciento y la población total ha aumentado un doce por ciento si me voy a rioja

del dos mil diecinueve oyón tiene un paro del veintiuno coma cinco por ciento labastida del quince coma cinco por ciento lanciego del catorce coma cinco por ciento

moreda el diez por ciento elciego diez por ciento puede ser estacional puede ser estacional

en ese momento hace un mes del paro

llamativos nos hablaba de la deslocalización de las empresas y aquí tiene mucho que ver la competitividad empresarial

estamos en la era de los datos hoy todo se puede medir con datos y con números también la competitividad

y los incentivos que reciben agitan les sale un mapa un mapa de los lugares del mundo donde la producción sale más rentable y allí van no tienen problema para deslocalizarse

tienen factores positivos y factores negativos y donde les salen los factores positivos allí van claro españa en ese mapa es que no aparece

no aparece ni con lupa en españa tenemos un problema el alto precio de la luz

los costes de producción y las deslocalizaciones claro y seguimos teniendo problemas con la productividad de las industrias

por lo tanto no somos competitivos este es un problema que viene de lejos que no lo resolvemos y si como decía a esto le añadimos las propuestas por ejemplo elevar el salario mínimo aumentar la presión fiscal ya nos han anunciado

presión fiscal que se aumenta a los beneficios de las empresas o seguir recargando con impuestos

pues las deslocalizaciones serán inevitables nosotros encantados de participar en esta ponencia esperemos que sea productiva y

nuestro grupo igual que han manifestado el resto de grupos que me han precedido es favorable a estudiar y a analizar la situación socio económica de aiaraldea y del alto nervión y también somos favorables después de ver la transacción y ya

a que se incluyan los municipios de orduña orozko arrankudiaga y arakaldo

aquí no es debatir si estamos a favor de crear una ponencia para una comarca digamos más o menos desfavorecida de euskadi sino para qué

nos va a servir para mejorar la vida de las personas eso es lo que nos tenemos que plantear crear una ponencia e incluso está mejor si se hace en campaña preelectoral es importante crear una ponencia pero no es suficiente yo más diría que incluso es insuficiente si el resultado de esa ponencia y el resultado del dictamen es el que hemos tenido con la ponencia de la margen izquierda y oarsoaldea

y nos crean no un plan de choque como ha dicho la proponente señora blanco sino un plan de poco choque como el que hicieron con la margen izquierda no estaremos haciendo nada

a la que se ha llegado se habla de la diversificación económica del sector primario del sector servicios de analizar la evolución del tejido industrial y eso es importante

y es importante también tengamos en cuenta aun así

a cómo va a producir la industria del futuro pero no a qué va a producir

y sin plantearnos que en la comarca de aiaraldea hay una industria que fabrica el ochenta por ciento de su producción

si solo analizamos cómo va a fabricar posiblemente estaremos

en su intervención que la empleabilidad no es sinónimo de bienestar y a mí me gustaría centrarme en el bienestar cómo se mide el bienestar de una comarca porque aquí ha habido una especie de debate

de empleo datos de población activa datos de producto interior bruto a nuestro grupo el producto interior bruto nos parece que es insuficiente para medir el bienestar de una comarca

como una comarca digamos razonablemente

saludable desde ese punto de vista yo quiero recordarle al señor tellería que municipios como aiala están en el setenta y tres por ciento del pib

okondo en el sesenta y nueve y orduña en el cuarenta y tres por ciento del pib orduña

de la riqueza media de euskadi pero esta ponencia va a analizar la situación socioeconómica

el análisis económico y no el social porque si analizamos el bienestar de la población tendremos que referirnos también a la salud a la educación a la vivienda al transporte a la dependencia la gente de la comarca de aiaraldea demanda un hospital comarcal

un centro escolar en llodio con más de un cincuenta por ciento de población inmigrante con una situación de segregación evidente no tenemos viviendas de alquiler social

la dependencia tenemos residencias suficientes para las personas mayores beraz garapen sozioekonomikoari buruz aztertu behar dugu

ha sido y cuál está siendo el papel de las instituciones porque nuestro país tiene un autogobierno muy amplio y ese autogobierno nos ha dotado de varias instituciones tenemos el gobierno vasco tenemos las diputaciones tenemos el gobierno de españa tenemos los municipios tenemos las mancomunidades y la cuestión es qué papel están jugando todas esas instituciones para mejorar la vida

tres ejemplos de la diferencia que hay entre que las instituciones cooperen o compitan entre ellos de que las instituciones hablen o de que las instituciones se den la espalda como a veces está sucediendo tenemos la cuestión del transporte y tenemos un municipio como orduña que es un enclave dentro de un territorio alavés a orduña le da servicio bizkaibus

tenemos por ejemplo presidencias en llodio y en orduña

hablan las instituciones para saber si hay plazas libres en llodio o en orduña para ciudadanos que no sean de ese territorio tenemos una depuradora de aguas residuales la de markijana

que están desde hace veinte años paradas porque las instituciones no son capaces de ponerse de acuerdo para construirlas hemos planteado hace menos de dos meses en este parlamento la posibilidad de que se hiciera una encomienda de gestión entre el gobierno vasco y el gobierno de españa para acelerar las construcciones de esas depuradoras por qué no se utilizan las herramientas que nos da el autogobierno para mejorar

el objetivo de esta ponencia más allá de analizar la situación socioeconómica tendrá que ser por un lado el de evaluar si el papel de las instituciones está siendo el que debería de ser el que sería esperable en un país moderno y por otro lado

la cuestión de los aspectos sociales que complementen a los aspectos económicos para llegar a un análisis completo un valle

no debe tener barreras ni geográficas ni administrativas lo que debe tener es puentes para unir a las personas que viven allí y las instituciones

y luego que se pongan de acuerdo entre ellas en quién paga los puentes pero la cuestión es cómo mejoramos la vida de las personas

su vecindad administrativa pongámonos a ello y seguramente a los vecinos y vecinas de aiaraldea les irá mucho mejor gracias eskerrik asko becerra jauna

señora corcuera estamos en un impás entre una campaña electoral y la siguiente la campaña electoral a las municipales

el día diez y ha bajado a hacernos un listado de cosas que habéis hecho los socialistas vascos

deberíamos de revisar los resultados de todas esas acciones porque si no seguramente no hubiera sido necesaria la creación de esta ponencia de la pnl habla muy poco de la fotografía de aiaraldea casi nada lo único que ha hecho ha sido

transaccional el señor tellería ha tenido la tentación pero es cierto que al final se ha centrado mucho más en nuestra propuesta incluso me atrevería a decir que ha sido bastante más con la comarca y con la situación de la comarca nosotras también podríamos haber hecho un listado de acciones fíjese que en esa comarca gobernamos en algunos municipios en otros estamos en la oposición y también hacemos varias cosas pero no lo hemos hecho porque creemos que hoy no tocaba no era el día

esa ponencia entonces vamos a dejarnos de logros y vamos a centrarnos en las soluciones que es lo importante

un listado y que haya revisado el trabajo de esta parlamentaria o de eh bildu

y hemos hecho unas cuantas acciones en diferentes instituciones desde el gobierno y desde

en laudio porque si a mí me preocupó poco a usted menos porque

al señor becerra solamente decirle que sí que se aborda la situación socioeconómica está en la transaccional recogida aun así cuando llegue el momento de la ponencia intentaremos centrarla para donde creemos que hay que centrarla y buscar sobre todo las soluciones

lo que nos preocupa y lo que compartimos con usted quiero terminar de nuevo

lo que hemos aprobado esa unanimidad de hoy y esperemos que esa unanimidad se refleje también cuando concluyan los trabajos de esa ponencia besterik ez eskerrik asko

la presidenta desde el escaño porque no pensaba intervenir pero como me ha sorprendido la intervención y la alusión de la señora blanco a mí sí me gustaría

alguna consideración en primer lugar clases de electoralismo hoy nos han dado ustedes alguna que otra

como alumnos que somos en algunas ocasiones aventajados yo desde luego no iba a dejar pasar la oportunidad

en esa comarca en la diputación foral de álava y también desde el propio

entorno de esos municipios aledaños a la comarca de aiara han estado trabajando y han estado luchando porque es verdad señora blanco en ninguna de las cuestiones y por lo tanto si a usted le ha molestado la verdad es que

es que es la verdad y la verdad le podrá doler a usted porque no sé qué tipo de objetivos

yo solamente he querido demostrar que había empatía con los problemas y las necesidades de la comarca de aiara por parte de los socialistas vascos y por parte de los socialistas

ha debido de entender el mensaje aunque no le ha gustado nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera

muy rápido porque tampoco pensaba intervenir en cualquier caso

que esto está teñido ya de un cierto pre electoralismo tanto desde la proposición que se trae una proposición presentada el dieciocho de diciembre se espera

para debatirlo y desde luego señor becerra hombre usted si lo que pretende es recuperar el chorro votos que han perdido en esa comarca en las generales

en vez de venir y criticar todo lo que no tiene esta transacción a la que hemos llegado todo lo que le falta todo lo mal que se ha hecho porque yo lo único que he intentado decir es simplemente que efectivamente puede tener algunos problemas más he hablado en global de la comarca si quiere hablamos municipio a municipio pero tendríamos que hacer una ponencia por municipios seguramente en cualquier caso yo he venido a traer eso no a sacar pecho absolutamente de nada

lo que hoy va a votar creo que sí se hiciera de otra manera en vez de esperar al día de hoy a decirlo haber presentado su enmienda y haberla trabajado y haber transaccionado y haber puesto usted por escrito todo eso que usted nos dice
que falta en la transacción muchas gracias eskerrik asko

de las dificultades que se generan con la constitución de una ponencia una cosa es lo que se firma y yo he dicho que vamos a votar nuestro grupo a favor de esto y otra cosa son las cuestiones que luego saldrán o no saldrán en esa ponencia y

de que no nos limitaremos a lo que se queda escrito lo que se queda escrito está muy bien votarlo la cuestión es

y claro que hay una serie de deficiencias no todos los municipios tienen las mismas deficiencias

a hacer ver que si bien los datos globales no son malos del todo hay municipios que sí se encuentran peor y hay cuestiones dentro de municipios que están bien

una convicción que es el que el comercio local el de los barrios

es el que realmente genera sociedad y genera comunidad en estos tiempos donde el neoliberalismo va contra todo lo colectivo

con esa lucha del todos contra todos las políticas públicas dirigidas al sector del comercio también se encuentran atravesadas desde esta perspectiva neoliberal

he hablado en multitud de ocasiones de eibar pero hoy volveré hacerlo eibar

habitantes un comercio local que agoniza hablaba hace unas dos semanas con una mujer recientemente jubilada y que regentaba una tienda en el centro de eibar

y esto es totalmente inasumible para los comercios locales y de proximidad en una ciudad como eibar más aun cuando ante esta realidad tenemos un corte inglés de diez plantas un mercadona y un eroski enormes

otro más grande y que no se nos malinterprete porque no estamos en contra de las grandes superficies ni mucho menos

que debemos defender y fortalecer un comercio local y de proximidad que da vida que da alegría que da empleo de calidad en nuestros municipios pero es que además

firmemente que el papel del comercio no debe ser el de fomentar el consumismo o eventos diseñados para una finalidad consumista

a disposición de la ciudadanía aquellos productos y aquellos servicios para la vida en su concepción más amplia incluida también la perspectiva medioambiental

económica del comercio también nos preocupan los impactos retributivos que existen

de grandes áreas comerciales y el comercio local

y quienes disponen de la propiedad y gestión de este comercio hoy dos de mayo después del día internacional de los y las trabajadoras debemos recordar que la lucha que sindicatos y trabajadoras

incide también en el apoyo al pequeño comercio que posibilita tener unas mejores condiciones salariales y unas mejores condiciones de vida y reitero

generan empleo de forma importante quizá en proporción de una forma menor que el comercio local pero

controlada para satisfacer las necesidades específicas de forma proporcionada y equilibrada sin embargo y como con casi todo las políticas que se implementan hoy en día favorecen más a las grandes

en definitiva perjudican a la defensa del pequeño comercio perjudican a la defensa de pueblos y ciudades vivas amables multifuncionales ciudades comercialmente justas socialmente equitativas culturalmente diversas y sobre todo generadoras de empleo local

el comercio local aporta vida a barrios pueblos y ciudades

y llena de movimiento en los espacios públicos da

una personalidad propia pero va más allá porque también ofrece productos locales

circuitos de consumo de corto recorrido y cómo no muchísimo más ecológico por todo ello nuestra iniciativa quiere incidir tanto

como en ayudar a potenciar ese comercio local

pero toda esta perspectiva que seguramente gran parte del arco parlamentario compartimos choca con una realidad que hay que corregir

diferentes asociaciones de comercio de euskadi han cuantificado el impacto que tuvo la crisis en el comercio local en la pérdida de cinco mil seiscientos establecimientos comerciales la mayoría de ellos pequeños

empleos entre las diferentes causas se encuentra la caída de los salarios y el poder adquisitivo de los mismos fruto también de la crisis y de las reformas laborales las políticas de grandes superficies el propio

como parte de una solución que debe ser más integral desde elkarrekin podemos proponemos

de corregir los impactos medioambientales y sociales que implican las mismas

como una forma de redistribuir recursos que el poder de mercado

se vea de una manera compensado con una intervención en la política pública que no arruine a los comercios locales por eso

a través de este impuesto un impuesto concebido como decía para que

negativo medioambiental y urbanístico que generan sea destinado íntegramente todo lo recaudado

del comercio local y de proximidad mediante un plan de apoyo realizado con la participación de las organizaciones representativas en este sector como sabrán también muchas de ustedes no estamos inventando nada nuevo este impuesto no es nada novedoso y

en comunidades como en nafarroa asturias aragón cataluña canarias o la rioja seguramente también sea conocido por muchas que las patronales de las grandes superficies comerciales

sin embargo tanto el tribunal de justicia de la unión europea como el tribunal supremo

en el caso del tribunal supremo por ejemplo en una sentencia firmada el diecinueve de septiembre del año pasado de dos mil dieciocho afirmaba que la finalidad de desplazar sobre los establecimientos implantados como grandes superficies las incidencias negativas que generan sobre el medioambiente

constituye un objeto constitucionalmente legítimo es decir que el impuesto que trae elkarrekin podemos hoy aquí a través de esta proposición no de ley

de la empresa y voy terminando me gustaría incidir en tres ideas que dan respaldo a nuestra iniciativa y que ya he comentado lo primero el impuesto de grandes superficies es una medida concreta para apoyar local y de proximidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades en segundo lugar no existe impedimento legal para aplicarlo muy importante en tercer lugar su recaudación que puede tener cierta relevancia alrededor de unos ocho o diez millónes de euros

esta recaudación a políticas que impulsen el comercio local y los empleos asociados al mismo y ya termino porque

el comercio de proximidad es algo pequeño en un mundo de globalización pero el poder está en las pequeñas cosas y está en la mano de cada una de nosotras poder

los superpoderes de las pequeñas cosas son aquellos que nos permiten construir futuro con un acto en apariencia tan normal como decidir cómo y dónde

pido desde esta tribuna que construyamos futuro que defendamos nuestro comercio local y de proximidad
esta proposición no de ley entre todas eskerrik asko eskerrik asko

bai eguerdi on berriro bueno en justa reciprocidad con la línea argumental establecida por

pero no lo voy a hacer sí me voy a abstener pero no por el momento sino por una cuestión de fondo en la que diferimos

y que ahora voy a aclarar al conjunto de la cámara guk pentsatzen dugu

konexioa esta es una cuestión compleja el definir el impuesto que se está proponiendo en la iniciativa de elkarrekin

y además hacer una ruptura entre la supuesta finalidad o las supuestas causas para la implantación

y luego dedicar la recaudación de ese impuesto a una finalidad distinta si es un impuesto finalista es un impuesto verde y tiene como carácter fundamental proteger el medio ambiente

debería ser con el objeto de que se proteja el medio ambiente y no de promover el pequeño comercio y ya digo estando de acuerdo con la

nos parece una fórmula que es jurídicamente equivocada y que solo llevaría

más que probable recurso y a una probable derrota judicial repito no por el impuesto en sí que como bien decía el portavoz de elkarrekin podemos ya ha pasado ese filtro es decir

poner un impuesto a las grandes superficies comerciales es legal y queremos

nuestra enmienda defendemos que se haga pero tenemos muchas dudas sobre

y utilizarlo para sostener al pequeño comercio aquí yo creo que hay que ser más imaginativos

que nos da la razón pero esa grabación ha sido obtenida de forma ilegal y por tanto no se puede aportar

no podemos utilizarla aunque moralmente nos dé la razón y aquí en este caso el objetivo loable de promover el pequeño comercio no se puede utilizar jurídicamente como razonamiento para imponer un impuesto a las grandes superficies porque entonces los tribunales no considerarían

regular el ámbito medioambiental sino que pensarían que es alterar la competencia que para mí no es sagrada pero en algunas instancias jurídicas de la unión europea sí lo es y hace que haya una legislación que evidentemente obligue a cuidar las formas por tanto sabiendo que queremos el objetivo de promover el pequeño comercio y sabiendo que queremos el objetivo de adecuar

a su realidad económica lo que no podemos hacer es establecer esa relación directa entre ese impuesto

hori da gure planteamendu integrala por tanto nos vamos a abstener no porque no estemos de acuerdo con la cuestión de la implantación de este impuesto sino por la forma es un impuesto que ya hemos respaldado en la comunidad de nafarroa es un impuesto en el cual en esa comunidad no tenía ese

podemos son literalmente apartados de ese impuesto por lo tanto evidentemente con esas partes que ya hemos respaldado en otra comunidad estamos de acuerdo pero

y ese planteamiento de utilizar el dinero para el pequeño comercio

si en el fondo se está de acuerdo y se podría plantear o hacer un planteamiento del tipo de si a través del impuesto hay una proyección de

que ya lo hemos pedido además de que se incrementen los recursos destinados a la promoción del sector del comercio pero entiendo que eso se puede hacer sin la inseguridad jurídica

de que este impuesto en caso de implantarse tal y como se nos solicita

sí gracias presidenta los socialistas vascos registramos junto con los nacionalistas vascos ante esta iniciativa de elkarrekin podemos

instar a las instituciones competentes a analizar en el seno del órgano de coordinación tributaria la fiscalidad vinculada al comercio

con la iniciativa de euskal herria bildu y hecho el análisis de los diversos estudios publicados sobre el impuesto

las sentencias del tribunal de justicia europeo y entendiendo a nuestro modo de ver que el gran adversario del comercio tradicional lo decía también antes pero

la gobernanza y en este caso lo que nos ocupa el tema de la fiscalidad nosotros entendemos que deben de ser abordados desde un enfoque

por tanto y considerando que debemos partir de un análisis de una visión amplia de la fiscalidad que afecta al comercio si del comercio queremos hablar el impuesto a las grandes superficies el ibi al comercio urbano

desde el ámbito de nuestras competencias y desde nuestra propia visión de las afecciones que la no imposición en los destinos de venta tiene una gran distribución

tenía mucho más sentido era más equilibrada era más amplia que la propuesta que realiza elkarrekin podemos desde abril de dos mil dieciocho ya se ha dicho aquí el camino a la imposición fiscal

por las tres sentencias del tribunal de justicia de la unión europea por la que se declara la compatibilidad de los impuestos autonómicos que gravan

de la unión europea y ha quedado claro que la libertad de establecimiento no se opone a estos impuestos

para determinar cuáles son los establecimientos gravados no es discriminatorio porque no perjudica a los nacionales de otros estados miembros cataluña aragón y asturias fueron las tres comunidades autónomas con este tipo de impuestos que soportaron el llegar hasta el momento de la sentencia

de justicia de la unión europea su finalidad en aquel momento tal y como lo tenían planteado en sus impuestos autonómicos era compensar

nada que ver con el tema del apoyo al pequeño comercio lo decía antes también el señor casanova la finalidad de ese impuesto a las grandes superficies ya que era un impuesto medioambiental

se trata de que redunde en beneficio del propio medio ambiente y de las propias externalidades que determinadas actividades como el comercio

del territorio hablando de la ordenación del territorio las grandes superficies que usted nos ha comentado

son superficies que están en tramo urbano superficies comerciales que están dentro de la trama urbana algo que estamos

entre los grupos parlamentarios de esta cámara como un objetivo ideal a tener es decir que no haya que desplazarse con vehículo propio fuera de las tramas urbanas y por lo tanto generar problemas medioambientales el tribunal

confirmó que estos impuestos tenían como objetivo contribuir a la protección del medio ambiente y a la ordenación del territorio tratando de corregir y compensar el impacto de esa actividad

por los flujos de circulación que se generaban mediante la contribución

a financiar medidas en favor del medio ambiente y de la mejora de las infraestructuras y aquí es me vuelvo a reiterar donde se plantean las dudas

los problemas que tenemos para poder apoyar la iniciativa que el señor bollain nos ha explicado

otra de las dudas que el tribunal supremo planteó al tribunal de justicia

era si las exoneraciones previstas por el impuesto autonómico basadas en las dimensiones de las instalaciones eran constitutivas

prohibidas por la unión europea y se han declarado que no lo son no son ayudas de estado y que solo podrían tener esa consideración si los establecimientos comerciales excluidos estuvieran en una situación comparable a las de los que sí están sujetos

debe ser el tribunal supremo quien compruebe que no se dan ventajas en la selección que se hace de qué establecimientos comerciales están exonerados y qué establecimientos no y qué actividad por su menor actividad comercial me refiero por su menor impacto negativo sobre el medio ambiente

o no y el tribunal de justicia europeo consideraba que en lo que respecta a cataluña concretamente a cataluña al resto

bien situadas pero en cataluña la diferenciación fiscal de la exoneración se entiende que sí constituye una ayuda de estado y otro asunto es el carácter como le decía finalista de este impuesto que plantea elkarrekin podemos y no porque

oportunidad y la necesidad de continuar promocionando el comercio local y de proximidad con un plan de apoyo realizado con la participación de organizaciones representativas en el sector sino porque los ingresos obtenidos por ese impuesto aplicado

no pueden ser destinados a ayudas específicas para empresas comerciales estamos ante un impuesto

establecimientos comerciales por la generación de externalidades negativas sobre el territorio sobre el medio ambiente y sobre el urbanismo para

por tanto no podemos estar marcando como finalidad por muy loable que nos pudiera parecer que esa sobre recaudación

por la aplicación de este impuesto podía ir directamente aplicado al pequeño comercio para el pequeño comercio

antes en la iniciativa existen programas existen planes estratégicos planes directores soluciones ayudas y programas consensuados con el sector que permiten seguir impulsando acciones en fomento y en promoción del pequeño comercio que efectivamente

pero el conjunto del comercio en el que también están integradas las grandes superficies no pueden entendemos nosotros verse

sino como le decía antes otro tipo de gravámenes e incluso el comercio electrónico que afecta también

aunque sea un tema transnacional no podemos dejar de tener una visión entendemos los socialistas vascos una visión propia por eso entendemos que debe ser el órgano de coordinación tributaria

en cargadas de establecer determinados impuestos en las instituciones forales o en caso del gobierno vasco quienes apliquemos o no dependiendo

en lo que constituye los impuestos transnacionales como en este caso

superficies plataformas como amazon etcétera etcétera de la distribución grandes empresas de distribución comercial y venta entendemos

proponer la regulación de este tipo de imposiciones y de fiscalidad a esas grandes plataformas que son quizás enemigo número uno

y del pequeño comercio también por eso no podemos apoyar su enmienda señor bollain ni hemos apoyado el primer punto de la propuesta de euskal herria

similar también es verdad que más específico pero que ya lo he explicado con anterioridad entendíamos

nuestra enmienda la cual votaremos a favor nada más gracias eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta la verdad señor bollain es que nos ha presentado una cosa

relativa a la promoción del comercio local y de proximidad y no hay ninguna propuesta que afecte en sus dos puntos ni al comercio local ni de proximidad su propuesta es cuanto menos contradictoria porque nos dice que

para gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que usted sabe y yo sé que se llama impuesto de sociedades que ya está gravado

y además dice porque provocan desplazamientos masivos consecuencia de sí pero usted el hecho imponible

ya están gravados ya hay un impuesto que los grava y yo no le voy a explicar

en concreto el señor casanova de la diferencia entre un impuesto medioambiental que grava y contaminar

y luego la finalidad que como usted sabe y yo sé los ingresos tributarios finalistas son las tasas usted paga

para pagar ese servicio y todo lo demás lo que se recaude da igual por cualquier impuesto es genérico y luego el gobierno de turno lo va a aplicar exactamente donde quiera por mucho que usted diga que sea finalista porque eso con perdón es así

el órgano de coordinación tributaria a ver está muy bien que opine todo el mundo pero esto es un impuesto de los llamados autonómicos es un impuesto que si se quiere crear es este parlamento el que lo tendría que crear no son las diputaciones forales ni las juntas generales

su competencia son los impuestos concertados no los no concertados o de nueva creación y por lo tanto no hace falta

nada relacionado con la creación de un nuevo impuesto medioambiental o no medioambiental que por supuesto que hay capacidad para hacerlo otra cosa es si es conveniente o no o cómo se plantea y por lo tanto

porque teóricamente es para favorecer al comercio minorista no hay ninguna medida para favorecer el comercio minorista

y luego lo tacha de medioambiental pero la finalidad tampoco es para el medioambiente con lo cual

es raro lo que usted nos ha presentado

yo sí le tengo que decir que si está a favor del comercio minorista a ver no hace falta recaudar dinero por ahí fuera para que el gobierno vasco lo aplique

si el gobierno vasco incumple hasta su propia ley de prórroga y las subvenciones nominativas que había para el comercio minorista se las carga

que luego no nos vengan aquí los representantes que apoyan al gobierno vasco diciendo que están muy a favor del comercio minorista porque eso es lo que está pasando hoy a día de hoy en este país vasco eso sí son medidas para favorecer el comercio minorista

y que están vigentes con la ley de prórroga el gobierno vasco las está incumpliendo

que se sienta ahí y es la que tiene capacidad no hace falta crear impuestos

a favorecer el pequeño comercio el comercio minorista y por supuesto qué quiere que le diga pero también discrepo un poco con bildu ahí es evidente que el comercio electrónico

pero también le tengo que decir una cosa si está a favor del comercio minorista lo que tiene que hacer es convencer a todos sus vecinos de que compren en la tienda de abajo porque todo lo demás

son pájaros y flores y es quedar muy bien pero si la gente se va a las grandes superficies o compra por internet pues como usted comprenderá

en vez de decir tanto que apoyamos el pequeño comercio como que realmente compremos en el pequeño comercio eskerrik asko

parte de una solución integral pero nosotros hemos traído una parte

desde un primer momento luego se ha hablado mucho y

yo sinceramente creemos que destinar la recaudación del impuesto finalista no tiene ningún problema en este sentido

y el planteamiento además de que esto pueda ser legal o no este encaje este planteamiento es algo que corresponderá a los órganos ejecutivos

señor casanova señora corcuera no sé cómo sin tener delante

pueden juzgar y pueden decir que esto no sería legal o que esto sería ilegal porque también entraríamos

creo que es realmente claro que es reducir el movimiento de vehículos y destinarlo a apoyar un comercio que tenga corto como prioritario ahí no hay un carácter medioambiental medioambiental

donde lo acotáis ustedes reducir

no es un paso medioambiental y luego señor casanova

al hilo del finalismo o no finalismo yo le he mandado una propuesta donde no decía

donde decía el parlamento vasco insta al gobierno vasco y a las diputaciones forales a que impulsen que la recaudación obtenida por dicho impuesto

eso es una manifestación política es que ustedes no quieren que lo recaudado por este impuesto se destine al comercio local y de proximidad

ese dinero va a una caja común y luego el gobierno de turno elige dónde destinarlo entonces podemos hacer una manifestación política de que ese dinero recaudado a través de este impuesto se destine al pequeño comercio local y de proximidad otra cosa es que ustedes no quieran por ejemplo firmar esta transacción con nosotros donde queda claro que es una manifestación política señor damborenea si hemos traído medidas para el pequeño comercio local que con este dinero se realice un plan

eso creo que es una medida bastante grande cuando hablamos de cantidades de millónes de euros por ejemplo en cataluña en el dos mil diecisiete catorce coma ocho millónes de euros un plan de digamos no catorce pero diez coma ocho millónes de euros para apoyar al pequeño comercio local yo creo

en asturias la recaudación cinco coma dos millónes en dos mil diecisiete en aragón ocho coma siete millónes yo creo que no estamos hablando de cantidades pequeñas y luego he visto cómo también el partido socialista el gran problema era el carácter finalista del impuesto porque vemos en aragón gravará las grandes superficies en murcia

lo mismo con este impuesto a grandes superficies se podrían recaudar más de ocho millónes de euros luego en euskadi

el gobierno aprueba el proyecto de ley foral de medidas tributarias que recupera el impuesto sobre

el problema está en el carácter finalista del impuesto pues si el problema está en el carácter finalista del impuesto

a que apoyen el punto número uno votemos por puntos el punto número uno

en aragón en navarra en la rioja en cataluña en asturias votemos por puntos aprobemos el punto número uno y luego ya veremos cómo los órganos competentes para ello los órganos ejecutivos

y en los parlamentos veremos que opiniones tienen los distintos grupos políticos
de las cámaras apoyemos el punto uno eskerrik asko bollain jauna

yo tengo absolutamente claro que hay que tratar y que hay que poner

porque es necesario porque es posible y porque es conveniente yo ahí no me escondo y es verdad que yo he dicho que el carácter finalista podría generar dudas jurídicas y podría generar

inmersa esta ley o este desarrollo fiscal en cuestiones judiciales que tarde o temprano acabarán por tumbarlo que es mucho más seguro recorrer el camino por separado para llegar al mismo sitio porque estamos de acuerdo en el mismo sitio que es

lo que no entendíamos es esa asociación que además de ser dudosa jurídicamente es de todo punto innecesaria y por tanto si fuera imprescindible

más recursos al comercio de hecho en el próximo pleno monográfico

en multitud de ocasiones traeremos todos esos temas y ahí sí que habrá que retratarse

se ha dado una razón formal aunque

que les gusta mojarse menos que a un gato porque no se trata que se lleve esto

porque es un tema de gran complejidad esta es la ley navarra es una ley

tiene una complejidad relativa lo que era complejo es que pasara el filtro

que se implante un impuesto para las grandes superficies otra cuestión es lo del comercio electrónico y ahí es verdad que con toda humildad hay que reconocer que hay cuestiones que son muy complejas

pues no ya asesores financieros sino auténticos ingenieros financieros destinados a que estas empresas paguen lo menos posible o nada si es posible

al órgano de coordinación tributaria algún tipo de estudio algún tipo de aproximación sin prejuzgar si va a ser posible o no hincarle el diente a la cuestión pero desde la voluntad

además de otras funciones también la de expresar la voluntad política de los grupos que lo componen y me hubiera gustado que los grupos que componen esta cámara

que el comercio electrónico tenga una imposición más efectiva y que hubieran manifestado la voluntad como manifiesta nuestro grupo y también el grupo proponente en este caso

más adecuada y tenemos el instrumento y tenemos el enganche legal cuando se ponía en cuestión las razones medioambientales

si queremos se puede y la unión europea ha determinado que estas razones medioambientales existen y ha determinado

como elementos no ya que contaminan directamente mediante emisiones sino que con su propia actividad

propuestas pues una serie de consumos energéticos y una serie de ocupaciones del territorio que efectivamente supone un perjuicio medioambiental que se puede tasar mediante la fiscalidad verde y eso es lo que estamos pidiendo aquí lo que no nos van a dejar es decir tú

superficies para dárselo a los pequeños comercios eso no nos lo van a dejar porque está en contra de la directiva de servicios y está en contra de la filosofía

de la sacralización de la competencia no me gusta pero es la que está en vigor actualmente y es la que va a determinar si lo que aquí aprobemos

ser breve señor bollain hacer el corta y pega a veces tiene consecuencias como la que usted nos ha traído hoy aquí el improvisar ahora el oiga pues vóteme algún punto a ver si salgo de esta historia

el punto primero porque usted quiere gravar la capacidad económica y no se puede

carácter finalista el impuesto a las grandes áreas de venta

a promocionar el comercio local y de proximidad mediante un plan de apoyo realizado con la participación de las organizaciones representativas en el sector

haciendo un quiebro llegamos a coger al comercio de proximidad aquí para ayudarlo decía usted claro nos están diciendo ustedes que esto es ilegal que es mira no no ni legal ni nada

dice que la ambivalencia de cataluña y asturias en el objeto del impuesto

desnaturaliza ese impuesto y la finalidad extra fiscal ordenadora de una conducta y por eso

el ánimo protector del pequeño comercio para el que deben continuar implantándose programas específicos para su impulso y desarrollo por el valor que representan en la actividad económica por lo tanto maestros tiene en fin los aplican pues aquí está y si quiere usted leer si le interesa

señor casanova decía hombre está muy claro qué queremos qué nos gustaría sí

su iniciativa primero y la enmienda ahora oiga pues no qué le vamos a hacer pues no ha salido entonces no tenemos la culpa

usted quiere dar un poco de leña a los amigos de la oposición pero tampoco le sale mucho

se lo hemos dicho en su iniciativa en el punto primero se lo décimos en el punto segundo el órgano de coordinación tributaria es quien puede o quien queremos nosotros este impuesto porque tiene capacidad como ha reconocido el señor damborenea tiene capacidad para decir analizar y reflexionar sobre qué es un impuesto

porque hay una múltiple variedad y gama de tributos que tienen que ver con el comercio y que no se están hablando hoy aquí o al menos hemos pasado por lo tanto ni el gobierno ni esta humilde parlamentaria tiene la culpa de que hoy no le haya salido su iniciativa de que hoy no le salga su propuesta ni votemos por separado ni lo votemos por conjunto es que no hay por dónde cogerla de verdad señor bollain yo

de verdad sus dos propuestas o son modificadas realmente

sería imposible entrar a hacer alguna propuesta como la que usted nos planteaba y vuelvo a insistir

de una huida por parte del gobierno hoy ha habido compromisos muy claros por parte del gobierno vasco hoy ha habido compromisos en materia de hacienda en materia de comercio y creo que son compromisos que no se habían conseguido hasta la fecha

por lo tanto ha habido una actitud proactiva por parte del gobierno para aceptar determinadas consideraciones a raíz de las iniciativas que ustedes habían presentado no creo que sea

gato huyendo del agua ni nada por el estilo señor casanova ha habido compromisos otra cosa es que usted

en el día de hoy y hasta el día que pasen las elecciones municipales le convenga reconocerlo nada más eskerrik asko corcuera

que es legal y lo hemos dicho y en ese sentido no hay ninguna duda lo que ocurre es que lo que usted propone es algo extraordinariamente limitado no solo ya por su finalidad sino porque única y exclusivamente lo que pretende es que se graven a las grandes empresas cuando nuestra propuesta y en justa reciprocidad

le pido que vote la nuestra la nuestra aunque es más breve pensamos que engloba

en la medida en que tiene en cuenta un aspecto que en el anterior debate de esta mañana nosotros nos hemos empeñado en intentar subrayar y poner de relieve

por no decir el reto más importante que tiene el pequeño comercio hoy en día es y la posición de los consumidores en relación a la compra de productos y servicios y es

que escapa a las administraciones fiscales vascas y pensamos que eso hay que dar una vuelta hay que darle una vuelta

nuestra propuesta es más completa la oct sí

ahora bien como aquí existen diversas administraciones fiscales que con un sistema y una metodología de colaboración y cooperación independientemente de

quien tendría que sacar adelante ese impuesto nos parece interesante que las demás administraciones fiscales

por eso décimos nosotros analizar y no pedimos a la oct que establezca porque tampoco le corresponde sino que bueno serían a las juntas generales en su caso

y la complejidad viene bueno no solamente por el propio impuesto en sí sino porque en navarra hay una única administración fiscal propia en cambio aquí hay más y por lo que acabo de decir pensamos que compartir todas estas ideas reflexiones y estrategia independientemente de que luego sea uno u otro quien lo tenga que aplicar nos parece interesante por lo tanto

a la iniciativa presentada por el señor bollain tampoco a la presentada por bildu

que evidentemente el comercio electrónico tiene que estar gravado exactamente igual que el resto del comercio sea electrónico o no sea electrónico y ahí esperamos que las diputaciones hagan su trabajo y hagan cumplir las normas fiscales que ya tenemos la oct a ver

está para coordinar las administraciones tributarias forales haciendas forales y evidentemente para hablar de la fiscalidad del comercio que es un órgano adecuado

cuando estamos hablando de crear un impuesto nuevo autonómico

no puede gravar un hecho imponible ya gravado ni por la

y usted quiere gravar la riqueza generada por las grandes superficies y ahí se le cae todo

bastante menos que las enmiendas que nosotros planteamos para incrementar el departamento de comercio más de dos millónes y medio de euros que el gobierno vasco no está ejecutando que está incumpliendo hoy

y los compromisos del gobierno vasco que nos decía la señora corcuera pues esperamos que sean cumplir sus propias leyes de presupuestos y ejecutarlas y las partidas nominales de comercio que se cumplan y que vayan a los comerciantes como estaba previsto en la ley cosa que no están haciendo

y hombre al partido nacionalista vasco que nos plantea una enmienda

la fiscalidad vinculada al comercio yo sin que analicen tanto si tanto les preocupan los autónomos tanto les preocupa el pequeño comercio